en castellano en las resoluciones de los conflictos en términos de política general se suele hacer referencia a las tres erres

son válidas reconocimiento reparación y garantías repetición y sinceramente creemos o diría que

y que el gobierno se ha visto obligado a reconocer aunque lo haya hecho a medias y señor darpón no se trata de buscar culpables no se trata de que rueden cabezas no se trata de intercambio de cromos ni maquillajes ni amenazas ni chantajes no se trata de eso se trata de aclarar lo de ir a la raíz y tomar medidas para que esto no suceda otra vez se trata de eso hasieratik

lehendakari joan da imagino que tendrá también cuestiones importantes sobre todo atar los últimos flecos en la negociación presupuestaria que considerará más importante en estos momentos puesto que ha salido con el señor azpiazu que estar en el debate sobre la creación o no de una comisión de investigación sobre las irregularidades de la ope bi mila hamasei bi mila hamazazpi en espero señor erkoreka que alguna apelación que voy a dirigir directamente al lehendakari

a las palabras que voy a decir los hechos que hemos conocido especialmente en los últimos meses evidencian una muy mala gestión

por ello este grupo el grupo popular ha planteado numerosas iniciativas

con el objetivo de su esclarecimiento y la asunción de las responsabilidades que correspondieran los sucesos

la actuación de los responsable tanto del departamento de salud

tienen que ver de forma muy significativa con las irregularidades de la ope

y con algunas otras cuestiones también conocidas recientemente

o el cese de la directora de salud pública entre los más significativos en relación a las irregularidades

de osakidetza dos mil dieciséis dos mil diecisiete este grupo ha censurado en numerosas ocasiones

la actitud de los responsables de la sanidad pública que intentaron en un primer momento ocultarlas luego minimizarlas

de forma rápida carpetazo por tanto estos hechos hay que calificarlos de muy graves y hay que otorgarles la relevancia que les corresponde porque evidencian sin duda que las cosas no se han hecho nada bien más bien todo lo contrario hay que decir que estamos

de gestión de este gobierno en un asunto que afecta a miles de ciudadanos y que también ha afectado

del sistema por la mala gestión de sus responsables hay que recordar que esta ope es la segunda más numerosa de toda la historia

personas yo quiero aprovechar esta ocasión otra vez para solidarizarme con todos los opositores que se han presentado a esta convocatoria pública

se han esforzado y que han visto sus expectativas frustradas sus opciones de conseguir un empleo en el aire y también

a todos los excelentes profesionales del sistema vasco de salud

que día a día desarrollan un excelente trabajo y que hace que tengamos

muy valorado por toda la ciudadanía vasca tengo que decir y volver a reiterar que este grupo no va a permitir que por la mala actuación de algunas personas y de algunos responsables se cuestione el sistema y se ponga en duda la honorabilidad de todos que hayan actuado correctamente ello conlleva para el grupo popular ser implacable con todo aquel que no haya actuado correctamente sencillamente porque no puede haber sensación de impunidad ante cualquier indebida con el fin de que quede alguna sombra de duda sobre el sistema hay que eliminar la posibilidad de que quede cualquier sombra de duda sobre el sistema

de evidentes indicios de irregularidades o mejor dicho

en algunas de las pruebas realizadas la información analizada y las conclusiones de las investigaciones realizadas así lo corroboran se ha constatado

y no solo me voy a referir a las especialidades médicas o me estoy refiriendo a las especialidades médicas

a cierta distancia del resto muchos son de los mismos centros y en la órbita de la persona que ha realizado los exámenes esta parlamentaria

ha preguntado en reiteradas ocasiones por varias cuestiones que tienen que ver con esta ope quién ha facilitado la lista de las personas que han hecho

sobre esta cuestión ha sido directamente interpelada

por ser la máxima responsable del órgano que proporciona la lista de los expertos que han realizado los exámenes y tengo que recordar y volver a lamentar que esta pregunta nunca ha sido respondida por la interpelada por qué se ha tutelado a los tribunales en algunas de sus decisiones de quién

realizadas incluso por escrito sobre la repetición de los exámenes por qué siendo los tribunales órganos soberanos

actuar como tales por qué algunas personas que han hecho los exámenes a la vez han formado parte de los tribunales e incluso

no era conocida por el resto de los miembros del tribunal

por qué hasta la fecha solo se han abierto ocho expedientes de investigación cuatro inicialmente

cuando las dudas de posibles filtraciones se ciñen a más pruebas cuál ha sido la motivación para la apertura de algunos expedientes disciplinarios

y en otros casos no aparentemente más graves y con mayores indicios para no abrir en estos casos expedientes disciplinarios este grupo viendo el desarrollo de los acontecimientos y especialmente la falta de autocrítica por una muy deficiente gestión por parte de los responsables de la sanidad pública vasca decidió presentar una interpelación sobre la intención del consejero de salud de realizar alguna reflexión y asumir alguna responsabilidad ante las irregularidades de la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete detectadas como todos ustedes saben

se presentó la correspondiente moción el martes treinta de noviembre instando a la asunción de responsabilidades políticas concretadas en la persona de la directora general

y control a este gobierno con coherencia y con seriedad y con la responsabilidad y el mandato que nos han dado los ciudadanos al estar representados en esta cámara el día quince conocimos el cese de la directora de osakidetza la señora múgica

se reconoce por parte del consejero de salud y el propio lehendakari que la situación generada en torno al papel de la dirección de osakidetza

era claramente insostenible el grupo popular ha manifestado y vuelve a reiterar y con dichos cese

una nueva etapa que conlleve un cambio radical en la gestión de dicho ente público es su oportunidad y esperemos

y no la desaprovechen porque en caso contrario nos veremos en la obligación de presentar nuevas iniciativas en esta cámara y a realizar nuevas solicitudes la iniciativa de creación de una comisión de investigación del grupo eh bildu fue presentada a finales del mes de julio activada ahora cinco meses después para ser hoy debatida en este pleno y no a lo largo de los meses anteriores en todo caso el grupo proponente

o habrá tenido para incluirla en el orden del día del pleno de hoy en donde también se va a debatir la moción de podemos en la que se pretende

en esta crisis en estos momentos como todos ustedes saben

investigaciones en el ararteko y en el ámbito de la fiscalía en donde se está llamando a declarar a numerosas personas entre ellas

ha declarado por ahora consideramos conveniente esperar el curso de las investigaciones y las conclusiones de las mismas para tomar nuevas decisiones entendemos además que con el cese de la directora de osakidetza se procederá a cambiar de forma radical

y de la dirección de recursos humanos en este tiempo de espera nos encontramos señor consejero máximo responsable de la sanidad vasca

como lehendakari de todos los vascos y el máximo responsable de este gobierno y lamento que no se encuentre aquí saben que tienen un problema ya han intentado frenarlo tomando la decisión de cesar a la directora

a petición del grupo popular espero que sean conscientes de su oportunidad y no la desaprovechen en su mano está por todo ello

planteada en la mañana de hoy por el grupo eh bildu eskerrik asko garrido andrea

la iniciativa que hoy nos trae eh bildu es una más de una serie de iniciativas que responden a la situación

hemos debatido sobre este punto muchas veces y muchos días

para exponer un estudio inicial y la última vez para poner encima de la mesa un documento de trabajo abierto a debate al trabajo y a las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios

que no vuelvan a repetirse situaciones como las que han sucedido entorno a las últimas oposiciones creo que en este objetivo

la posibilidad de aprobar la creación de una comisión de investigación ha estado sobre la mesa desde el primer día que salta esta situación es una posibilidad que en este parlamento

por supuesto la posición del grupo parlamentario que la propone eh bildu desde el grupo socialista entendemos que en este caso el procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido diferente

con la misma posición que hemos mantenido desde que se tuvo conocimiento de la primera sospecha de irregularidades el pasado mes de junio la que nos llevó a respaldar una posición unánime de esta cámara en siete de ocho puntos sobre lo que había que hacer

entendemos que no debemos jugar con el futuro de tantas personas que se han preparado para acceder a un empleo no vamos a jugar con el cuestionamiento de este servicio público

porque lo que está en juego es mucho más que lo que podamos plasmar en un discurso político que luego pasará al diario de sesiones no vamos a jugar a generalizar ni a acusar

entendemos que no se ha mirado para otro lado se ha expuesto el asunto se ha debatido se ha discutido y esperamos que acabemos acordando entre todos

el gobierno ha ido cumpliendo cada una de las exigencias que esta cámara marcó ha ido explicando cada uno de los pasos a dar

el asunto incluso estas personas han participado en las comisiones parlamentarias esperamos a solucionar lo urgente y que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que no haya la más mínima sospecha sobre la limpieza de esta o cualquier otra convocatoria de empleo la garantía de igualdad de oportunidades

se dan por supuestas y desde luego tienen que ser una exigencia garantizada este parlamento

hay una propuesta concreta abierta a todos los grupos parlamentarios de esta cámara a los colectivos sindicales

para garantizar que las próximas pruebas ya comprometidas se hagan con el máximo rigor la máxima limpieza y la máxima seguridad esta es la tarea que pedimos

y en la que nos hemos comprometido en esta cámara es la que va a seguir empeñado el grupo socialista en lo urgente

en que pueda seguir convocándose ofertas de empleo sin riesgo de sospecha

y desde luego no aceptamos ser coparticipes de ningún fraude de ningún amiguismo y por supuesto de ninguna defensa de la impunidad en esa urgencia no está hoy la creación de una comisión de investigación a criterio del grupo socialista

es porque hoy doce de diciembre no vemos una razón distinta de la ya explicada porque esta comisión se registró como ha dicho la señora ubera el pasado veintitrés de julio

pero se ha elegido esta fecha de hoy coincidente con otro debate posterior que hablaremos de la

por parte de elkarrekin podemos defendemos la necesidad de transparencia

la exigencia de trabajar por evitar situaciones como estas en este caso no vemos la necesidad de una comisión de investigación

situaciones en esta cámara acaba judicializándose en el parlamento lo que ya está hoy en la fiscalía

diferentes a la de los últimos cinco meses para evitar esta iniciativa

para garantizar la limpieza en futuras convocatorias

es conocido por todos que los socialistas siempre hemos trabajado en cualquier comisión de investigación creada en esta cámara y aunque por lo que nos ha anunciado la señora garrido parece que no se va a activar si así fuera volveríamos a hacerlo sin prejuicios y sin excusas pero seguimos pensando que de crearse esta comisión el momento oportuno para hacerlo

diseñar un modelo más garantista para las ope que tenemos en cartera

seguimos creyendo que es lo urgente por tanto el grupo socialista reconoce la importancia de este asunto y es por eso que también apoyamos en su momento la hoja de ruta que proponía exigencias concretas al gobierno

para mejorar el sistema que hasta hoy ha estado en marcha defendemos la transparencia y la información y esto no se debe poner en duda por el no

respetamos el trabajo que se está realizando en el gobierno en el parlamento y por parte de la fiscalía sin olvidarnos de la investigación puesta en marcha por el ararteko empezamos este debate antes del verano poniendo en valor por un lado a quienes se habían presentado a los exámenes que desde luego deben ser nuestra primera preocupación porque hay quien ha paralizado su vida para querer forjarse un futuro

y que los ciudadanos valoran como primera institución dentro del gobierno vasco

trabajo de sus profesionales sin permitir que se ponga en duda su profesionalidad

porque no se puede decir esto lleva ocurriendo cuarenta años y ha pasado siempre como si los cargos que tienen alguno de los médicos de osakidetza hayan sido regalados por esos amiguismos por esa

y por ese fraude que parece que ha sido una generalidad dicho todo esto como a nadie le extrañara el grupo parlamentario socialista votará en contra de la propuesta de eh bildu pero como hemos dicho en caso de salir adelante trabajaremos de forma responsable rigurosa y seria para que esta comisión cumpla los objetivos que se marquen la señora ubera terminaba su intervención con dos conceptos repensar y reflexionar desde luego el grupo socialista comparte

qué se ha hecho mal hasta ahora y desde luego nos obliga a reflexionar sí pero desde luego para aportar y no para reventar

es que se están utilizando para beneficios partidistas para llenar páginas

y desde luego lo único que está ocurriendo es que se está poniendo en entredicho el sistema público vasco por tanto

junto al gobierno para poder hacer de esto la última situación que ocurra respecto a una oferta pública de empleo de momento en esta primera intervención nada más que decir pero esperemos que a partir de ahora nos encontremos debatiendo para consensuar y no debatiendo en un diálogo de sordos que es lo que
empezó a convertirse desde el primer momento todo lo que ha tenido que ver con las ope de osakidetza eskerrik asko rojo andrea

egun on mila esker presidente andrea eguerdi on guztioi pues vamos a seguir intentándolo porque el pasado diecinueve de julio comparecía en este parlamento el señor darpón para dar cuentas de las irregularidades de la ope de osakidetza

médicos habían denunciado y que el acta de mi grupo elkarrekin podemos venía a corroborar ese mismo día yo misma manifesté la necesidad

a todo lo que había sucedido era necesario crearla

y quedar patente que su único objetivo era el de castigar a quienes habían hecho la denuncia y tapar todo rápidamente

es decir de conceptos sicométricos no cabe duda que los exámenes son ampliamente mejorables pero de lo que se estaba hablando era más serio que todo esto estábamos hablando de filtraciones y el máximo responsable del departamento de salud trataba de tapar y pasar página cuatro días después eh bildu registraba esta iniciativa que debatimos hoy doce

cinco meses después en la justificación de esta proposición no de ley leemos

pero el gobierno se ha negado a ir al núcleo de la cuestión a investigar qué y quiénes han posibilitado las irregularidades a determinar y depurar responsabilidades a adoptar medidas que garanticen su no repetición y sigue

si se pretende acabar con la impunidad hay que investigar asimismo donde falla el sistema para posibilitar todas

mencionadas es imprescindible saber dónde están las grietas para adoptar las adecuadas medidas correctoras es un trabajo que imprescindiblemente hay que realizar

de que el gobierno se está negando a ello pensamos que lo debe realizar el parlamento es por lo que se proponía la creación de una comisión especial de investigación a fin de que se esclareciese las irregularidades detectadas en la ope pública de empleo de osakidetza y determinar responsabilidades que pudieran derivarse de ellas

estamos todas de acuerdo y elkarrekin podemos inmediatamente declaró su disposición a apoyar esta iniciativa lo que no entendemos es porqué se han tardado

sabíamos que no era cuestión de tiempo en estos meses no ha cambiado nada para que sea ahora y no en septiembre cuando exista la necesidad

lo mismo que pensábamos en julio pensamos ahora necesitamos una investigación que hable de filtraciones de una vez

sin matizar que cualquier manto pueda cubrir vamos tarde

que necesitan una explicación y sobre todo una solución

en la apertura de ocho expedientes informativos en problemas de correcciones en la dimisión forzada de la anterior directora para no condicionar la política del gobierno y en un informe

y sin embargo a día de hoy no sabemos qué pasó se ha dejado un tiempo preciosísimo para todas esas personas opositoras condenadas a repetir el examen con las mismas oportunidades con las que lo hicieron la primera vez ninguna con los mismos tribunales y con el mismo modelo corrupto y mafioso que se ha utilizado hasta la fecha además culminando esta ope se da por bueno este modelo que no es otro que el preseleccionar a quienes van a superar la ope

especialidades que para no hacerlo con otras o para recomendar la repetición que para valorar que no hace falta volver a realizar las pruebas el pasado seis de junio pedíamos que la investigación en marcha llegase a sus últimas consecuencias

que procedieran la primera reacción del gobierno fue cuestionar mi honestidad y negar cualquier tipo de irregularidad cualquier tipo de irregularidad optaron por el ataque y la negación de lo ocurrido se vislumbraba ya que no existía ningún tipo de interés por contarnos qué había ocurrido en la ope bi mila hamasei bi mila hamazazpi de osakidetza

y se procedió a abrir expedientes informativos de algunas especialidades motivados por las evidencias que ofrecía la estadística y por otro tipo de actuaciones como denuncias públicas de dos miembros de tribunales de cardiología y angiología

cinco meses después sabemos que el miembro del tribunal de cardiología

antes de que se celebrase la prueba y nadie hizo nada también sabemos que parte del tribunal de angiología señaló a una de sus miembros como la persona que filtró

que ella misma había diseñado y a pesar de ello la mantiene como miembro del tribunal que debe repetir la prueba y sin embargo nada de esto nos ha explicado el gobierno

soberanía e independencia de los tribunales cuando todos ellos están intervenidos por un miembro de osakidetza no facultativo

incapaz de detectar filtraciones mientras se mostraba como abanderado de la transparencia en osakidetza

en intentar ocultar lo que todo el mundo sabe que existe una práctica corrupta

una práctica normalizada y asimilada por quienes trabajan en osakidetza de forma y que esperan que llegue su momento para poder optar a ella lo que ha quedado patente es que si algo ha hecho el gobierno es proteger este modelo ope tras ope ya lo dijo el señor darpón no es mi primera ope

y del departamento de salud y es por ello que no han querido más que ocultarlo tras un catálogo de mantos

pagar el pato a unos pocos informes psicométrico que servía de coartada para que el gobierno pudiera apoyarse en algo y lo contrario con el mismo

informe del cambio de modelo que pretende blanquear las irregularidades porque no me imagino que se pueda mejorar nada sin tener a priori un diagnóstico de lo que falla

videos de cuarenta y ocho mil setecientos euros actos conmemorativos conferencias y exposiciones

lo dijimos el seis de junio y lo décimos hoy también

más transparente y democrática el gobierno no ha querido investigar solo ha querido tapar el modelo y como más vale

hoy también creemos que es necesaria la creación de esta comisión para que este parlamento investigue

todo lo que el señor darpón se ha negado a dar a conocer por eso

creemos nuestro grupo piensa que esta ope se ha organizado de forma transparente y con todas las garantías previstas en la ley pero que han surgido

por eso ante las dudas que se han generado en los últimos meses en relación con la posibilidad de que haya habido irregularidades en el proceso selectivo desde el primer momento desde nuestro grupo

para esclarecer lo ocurrido hasta sus últimas consecuencias

esta situación para poder finalizar el proceso selectivo con garantías y transparencia sin embargo también le instamos a actuar

objetivas preservando en todo momento tanto los derechos del conjunto de personas opositoras

compañeras y compañeros de todas esas personas que han participado en las respectivas oposiciones y que no se nos olvide

las prorrogativas de la administración con la capacidad de actuar que tiene el gobierno

son limitadas y son estrictamente las que le permite la ley el ordenamiento jurídico

también le instamos a que además de la investigación interna colaborara con el ararteko y con la fiscalía tal y como lo ha hecho por iniciativa propia desde el primer momento

ditugu se ha hablado de modelo corrupto mafioso y hasta franquista

de quedar en hoteles para pasarse sobres con las preguntas

algunas han hecho acusaciones gravísimas de filtraciones basándose en indicios sospechas y supuestas quinielas que han convertido en pruebas concluyentes

a determinados jefes de servicio que formaban parte de tribunales de la ope

porque ya tienen dictaminadas sus conclusiones porque ya han dictado sentencia condenatoria precisamente bajo el pretexto de que no ha sido posible demostrar

tal y como ellos mantienen lo cierto es que el resto les da igual todas las actuaciones

todas las explicaciones le son indiferentes porque les mueve únicamente su interés por desacreditar y obtener un rédito político de esta desafortunada situación

el primer grupo que solicitó la asunción de responsabilidades políticas concretas para que se asumieran por parte de este gobierno y además las concretamos en la persona de la directora general de osakidetza y la asunción de esas responsabilidades políticas o se asumieron y se cesó a la directora general

haciendo caso o cumpliendo la petición exacta del partido popular que puso encima de la mesa en ese momento

he dicho en mi primera intervención la situación nosotros la hemos considerado de muy grave creemos que la actuación del departamento de la directora general de osakidetza ha sido muy deficiente

mejorable en relación a toda la gestión de todas las cuestiones de las irregularidades

y es que encima que es lo que he tratado de hacer en mi primera intervención muchas cuestiones

que estaban sobre la mesa en relación a las irregularidades de esta ope iban directamente

como máxima responsable de este ente tengo que decir y vuelvo a repetir la señora directora general de osakidetza la exdirectora señora múgica

sin contestar a una respuesta que tenía la obligación y la responsabilidad de contestar como era responder a la pregunta de quién había dado los nombres de los expertos o de las personas

pregunta y la respuesta correspondiente no es baladí señorías por qué digo que no es baladí y no es absolutamente inocua porque las personas aprobadas y las personas que han podido obtener una plaza y que han aprobado

estaban absolutamente cercanas y en la órbita concentradas en ciertos hospitales y en la órbita de aquellas personas que han hecho los exámenes por lo tanto hay una responsabilidad directa en la persona

que de osakidetza partieron esos nombres esa lista de expertos que hicieron los exámenes por lo tanto creo que todo apuntaba

a la asunción y a la necesidad de la asunción de responsabilidades en este caso de la máxima responsable de la realización de esta ope y de gestionar esta ope eso sí

con esta dimisión con este cese mejor dicho de la directora general de osakidetza avalado obviamente por el señor consejero

hemos dicho ustedes tienen una oportunidad eso sí o la aprovechan

desde luego el partido popular volverá a tomar la iniciativa como lo hicimos cuando solicitamos expresamente y tengo que decir que es el único grupo que apuesto sobre la mesa una petición de responsabilidad concreta en la persona de la directora general

que cesó y hoy es exdirectora general de osakidetza

no se puede venir aquí y yo creo que ustedes tienen que hacer un autocritica sí que son el partido nacionalista vasco

se creen que son inmunes que además

sensación de impunidad y creo que ese mensaje no es bueno trasladarlo a los ciudadanos

les afectan actuaciones y hechos que tienen una gravedad clara y que además han demostrado una muy mala gestión

de sus responsables políticos hay que tomar decisiones y por eso el partido popular puso sobre la mesa la decisión de tomar responsabilidades políticas en una persona concreta que fue la directora general de osakidetza por lo tanto

cualquier intento por parte del gobierno me estoy refiriendo especialmente al partido nacionalista vasco porque es el que tiene la consejería de salud no puede venir a justificar actuaciones de un gobierno porque la prueba más evidente de que las cosas no se han hecho bien y no se han hecho nada bien ha sido que han tenido que cesar

es que la han tenido que cesar por lo tanto tampoco pueden venir aquí diciendo que aquí no ha pasado nada

muy alto y muy claro que este grupo tomara la iniciativa y obviamente planteará nuevas propuestas si en su caso son necesarias

presidenta me parece bastante irresponsable señora macazaga utilizar en una tribuna parlamentaria

procedimientos mafiosos y luego todo esto unido a no sabemos qué pasó

por unanimidad siete de ocho puntos por parte de todos los grupos parlamentarios

todo lo que fundamentalmente elkarrekin podemos eh bildu y el partido popular solicitaban al gobierno y que los partidos que lo apoyamos

vuelve a ser irresponsable diciendo que es una práctica normalizada poniendo en entredicho la profesionalidad de los

y al final de mi primera intervención decía yo que estábamos ante un debate de sordos es que da igual lo que digamos en torno a este tema

que puede ser la dimisión del señor darpón a iniciativa propia

o la reprobación por parte de esta cámara que es lo que vamos a debatir luego

por tanto da igual lo que digamos se pone en cuestión el informe psicométrico poniendo en cuestión la profesionalidad de la persona que lo plantea se dice que no se ha hecho nada cuando se han reunido con ustedes a puerta cerrada el gobierno a puerta abierta en comisión parlamentaria

es que se ha hecho todo ustedes han tenido acceso a toda la información de lo que tiene que ver con esta

lo comprendo entiendo que no estén de acuerdo con los resultados que puede estar ofreciendo el gobierno

es que no se ha hecho nada intentando trasladar a la ciudadanía que hay dos partidos en este parlamento vasco que han cerrado los ojos y se han puesto una venda entendiendo que da igual lo que suceda

no le voy a permitir y luego decía la señora ubera es que

enmienda transaccional mire señora ubera en este parlamento en este pleno de hoy ha habido un cambio en el orden del día del pleno y no lo ha pedido ni el pnv ni el partido socialista de euskadi

obviamente hay una atención mediática mucho más si es el primer punto que es el sexto o el quinto que todos sabemos cómo funcionan también los medios de comunicación

tengamos barrido nuestro portal y usted decía tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos y ustedes también

porque están creando frustración y haciendo con este tema demagogia

le he respetado y he oído bastantes tonterías en su primera intervención y le diré más usted dice
estar a favor isiltasuna ubera andrea isiltasuna

y no apoyar la comisión de investigación es que son dos cosas diferentes señora ubera usted sabe para qué se quería utilizar la comisión de investigación de este parlamento para judicializar hay una investigación abierta del ararteko otra en el gobierno
y otra en la fiscalía por cierto llevar a la fiscalía lo pidieron ustedes en la ubera andrea

y hay que dejar actuar no quiere decir que no querer investigar porque es que a partir de ahora entonces para todo lo que queramos investigar que hay mucho en este país

quieren investigar lo que a ustedes les interesa y decían ustedes la voluntad es ir hasta el final

pero no se puede utilizar el esfuerzo de los ciudadanos y el buen nombre de

dije creo que debiéramos de bajar el tono de las afirmaciones que se hacen en los discursos porque debemos ser responsables

y poner en manos de los ciudadanos una solución para que esto no vuelva a suceder porque creo tener buena memoria

él mismo dijo tengo un problema no negó lo que había sucedido negó que efectivamente algo se ha hecho mal pongámonos a trabajar para buscar soluciones pero no le digamos a los ciudadanos cosas que no son ciertas porque ustedes saben que es que nos hemos reunidos todos los grupos parlamentarios con el gobierno sabemos la información que nos han dado

y usted decía claro es que ahora traen el informe de jiménez asencio y el gobierno no lo asume y yo le pregunto señora ubera

este informe lo ha hecho el gobierno lo que se pretende es traer un informe realizado por un profesional que además explicó desde qué punto de vista venía y ahora está abierto para que todos digamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal

tenemos una fecha para entregar las aportaciones de los grupos parlamentarios

yo entiendo que no se está de acuerdo cada partido con lo que el gobierno está haciendo yo lo entiendo son los partidos de la oposición pero lo que no se puede decir es que no se ha hecho nada

que no hay información y que encima retiramos enmiendas no sé por qué
amaitzen joan rojo anderea perdone otros se han pasado en casi dos minutos

hablando de corrupciones de actitudes mafiosas cuando sinceramente aquí solo hay un fin que yo

pero solo aquí hay un fin que es acabar con el consejero de salud y entonces vamos hasta el final y si ustedes lo tenían tan claro haberlo

tres meses debatiendo buscando titulares de periódico para que esto no acabe porque las municipales están cerca y aquí hay intereses políticos

no se puede conformar usted con la depuración de responsabilidades en la dimisión de la señora múgica

porque no se esclarece nada y segundo porque igual no es ella en quien debe recaer la responsabilidad o toda la responsabilidad señora rojo vaya papelón me gustaría saber

dígame usted en otro momento ahora ya no va a tener turno de palabra qué investigación está llevando el ararteko por favor porque el ararteko no sabe qué investigación está llevando el mismo me lo comenta luego

señor orbegozo qué problemas surgieron en esta ope se lo pone usted bien difícil al señor darpón desde luego miren

el problema es que no lo ejecuta lo único que pone al descubierto es que no se quiere que la ciudadanía se entere de nada y las filtraciones

y pasen a la historia como tal cuando todos y todas sabemos que las filtraciones son una realidad en la ope de osakidetza y así lo constata la caída de la anterior

debemos estar vacunados no ante la gripe solamente sino también ante

a la opacidad al oscurantismo o como ustedes prefieren llamar a la discreción existe un problema si no son capaces de asumir que se vulneró

se vulneró la igualdad de oportunidades y el gobierno quiere que pensemos a problemas como usted llama o a modelos de corrección se aceptó un modelo corrupto que permite elegir a quienes van a superar la ope antes incluso de ser diseñado el examen

por ello que el gobierno no ha querido investigar sino tapar sus propias vergüenzas

suficiente para investigar si hubiese tenido voluntad

se han hecho pseudo investigaciones a unas categorías en detrimento de otras los mismos parámetros que el departamento de salud determinó como válidos para investigar esta arbitrariedad

con ciento veinte opositores para cincuenta y cinco plazas a las que aprueban cincuenta y seis con todas próximas a cien en la prueba práctica

de alto deba mondragón el servicio lo forman ocho personas

tres son fijas y dos de ellas miembros del tribunal las otras cinco personas son interinas y obtienen plaza con notas superiores a noventa elkarrekin podemos

que estas cinco personas iban a sacar la plaza fechas

el informe de la universidad de oviedo señala que la distribución de las puntuaciones no se ajusta a una distribución normal

esta se decide que no se repite y todo queda en una bronca al tribunal independiente soberano y autónomo por haberse reunido informalmente como si fuera el primero que lo hace quiero recordarle que en uno de sus expedientes informativos aparece

un claro ejemplo del porqué de la existencia de una segunda prueba en las ope de especialistas según el informe

no se ajustan a una distribución normal sin embargo esta vez se pasa por alto y no se utiliza como elemento determinante para recomendar su repetición se presentan treinta y nueve personas para catorce plazas aprueban catorce y podríamos mencionar otras tantas y tantas que han quedado sin resolver por un único motivo

ha habido voluntad igual es que ustedes tienen más información que yo y conocen lo ocurrido para lo cual no necesitan ningún tipo de investigación díganme

no se filtró qué especialidades hay afectadas por estas prácticas clientelar sí clientelar y corrupta

qué saben ustedes que no sepamos nosotros que no necesitan ninguna investigación porque la ciudadanía y elkarrekin podemos necesitamos saber qué ha ocurrido tenemos muchos indicios que corroboran lo que yo aquí digo el parlamento debe tener la capacidad de poder investigar y sacar a la luz todo lo que el gobierno ha querido ocultar sacar sus propias conclusiones depurar responsabilidades y también tener la oportunidad

señora macazaga atrévase de una vez no venga siempre

con el mismo rollo diga los nombres haga públicos los nombres aquí atrévase

esa gente públicamente de una vez es que ya vale es que ya vale a usted le da igual que haya habido filtraciones o no es que le da igual

al igual que no es posible demostrar que no las ha habido y ese es el problema

vivimos en un estado de derecho y la gente tiene derechos y existe la presunción de inocencia

la consejera macazaga iría donde esas personas les arrebataría el teléfono móvil miraría sus whatsapp fisgaría

miraría todas las cámaras pondría micrófonos etcétera etcétera

pero no es lo que vamos a hacer nosotros confiamos en el estado de derecho confiamos en las competencias que tiene el departamento el gobierno

dar caña al gobierno dar caña al pnv y aquí las únicas responsabilidades políticas que se van a dilucidar lo que va

va a ser en las elecciones lo que van a votar porque esto realmente

la gente no lo entiende lo que ustedes están haciendo es un abuso y no lo entienden

egun on guztioi se propone que la perspectiva de género aparezca nombrada como un compromiso de carácter transversal que afecta a la complitud y no tanto listada como un área más de las políticas públicas dado que no es un área como tal dado que es una aportación genérica estratégica y sustancial la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero para la igualdad de mujeres y hombres señala en su artículo tres punto cuatro como principio general

han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover

repito atraviese todo el plan para que se considere de modo sistemático las diferentes situaciones condiciones aspiraciones y necesidades tanto de mujeres

en este sentido la perspectiva de género va más allá de aplicar algunas medidas concretas dirigidas a las mujeres se trata de promover la igualdad de modo activo anticipando las posibles efectos diferenciales o impactos de género de toda la actuación de las políticas públicas familiares en la vida de las mujeres

chicas y chicos que se articulan a través de este plan todo ello

al contribuir a dar respuesta a una mayor amplitud de la realidad social existente estas no son mis palabras son palabras textuales de emakunde

aprobado por este gobierno concretamente es la página tres y quien necesite

desde el que entendemos que este es un tema central que hay que abordar

a la consejera hace dos semanas con la que proponemos un objetivo ambicioso a la altura del compromiso que tiene elkarrekin podemos pero que entendemos debería ser común al resto de fuerzas de esta cámara no implementar políticas públicas con sesgo patriarcal

en nuestra opinión eso pasa por reconocer que el departamento de empleo y políticas sociales en este caso aunque la consejera igual no le apetece escucharlo tiene

como elementos troncales en las políticas a que se introduzca la perspectiva de género

instamos a adecuar las políticas públicas para asegurar el ejercicio de derechos por parte de las mujeres partiendo de una evaluación diagnóstica de los servicios

que dé pie a una estrategia integral que consideramos urgente esta proposición entendemos que se ve enriquecida con las aportaciones de la enmienda de adición que ha realizado la señora etxebarrieta proposición que traemos sobre la mesa por dos razones

y así es como nosotras reconocemos que podemos mejorar la acción de este gobierno

número de materias entre sus responsabilidades que son indispensables valorar con perspectiva de género no solo para garantizar su efectividad sino por el propio sentido de las políticas públicas de los recursos y de los servicios y a día de hoy encontramos muchas carencias señalo algunos ejemplos no se pueden ni se deben seguir planteando políticas de familia viendo el género como un cajón estanco no se pueden ni se deben plantear políticas de infancia viendo el género como un indicador de cuántas niñas y niños y a día de hoy es en gran medida lo que se hace

pero eso no es suficiente urge un cambio no se puede ni se debe hacer políticas sin mirar a las mujeres porque somos la mitad del mundo más allá de desagregar los datos entre mujeres y hombres es preciso

y es por eso que agradecemos también los matices de la enmienda de eh bildu medir el impacto que las políticas están teniendo de forma específica en las mujeres y esto a día de hoy no se hace no solo es indispensable sino es que además están en nuestra mano cambiarlo

que no es que no mire a las mujeres es que directamente borra a la mitad de la ciudadanía nos invisibiliza y diseña políticas que en el fondo son inaccesibles

dejan a tras a muchas mujeres no soy yo es el propio ararteko quien dice en

de forma desproporcionada y o no ajustadas a derecho

no se deben porque poder están pudiendo promover cuestiones como las

con peores contratos y menor poder adquisitivo donde sin duda estamos las mujeres

no se puede ni se debe aumentar los montos de ayudas económicas que contribuyen a que sean las mujeres peor remuneradas las que se queden en casa como si el cuidado fuese solo cosa nuestra

presentar planes sin hacer el informe de impacto de género he buscado

y sin éxito también he preguntado de nuevo por si acaso no era yo capaz de encontrarlo pero resulta que aparentemente no existen o si existen no están accesibles los informes de impacto de género

pero no se preocupen no voy a darlo por hecho voy a pedirlos todos salir de dudas y espero hacerlo positivamente permítanme no obstante que cuestione y ponga sobre la mesa que me preocupa que este gobierno no esté

no podemos permitir aunque ya se haya hecho que el grupo político que sustenta esta gobierno junto con el pse que tanto pecho saca por la igualdad

ya no existe violencia machista ni violencia de género de un plumazo borran ustedes una realidad

a los ojos sino que está más allá de la violencia en el ámbito

por si no lo saben existe un sinfín de violencias más allá

del hogar pero es que aunque escueza tengo que decir que este departamento no se está ajustando a principios como el de igualdad y no discriminación no está promoviendo el valor de la equidad o el de la proporcionalidad y esto en un ámbito como el de la pobreza que tiene rostro de mujer nos perjudica de forma específica

con cuatro hijos tres de ellos con una discapacidad extinción a una mujer por dejar un empleo ante una situación de embarazo de riesgo que hoy mismo están denunciando colectivos sociales en barakaldo

se le antoje que deben de cumplir unas normas que no existen y no lo digo yo

el ararteko la sensación es que aquí se tira para adelante cual burro con orejeras sin mirar a quien se cae por el camino sin preguntar porqué se caen por el camino

a cualquier ser humano máxime cuando nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad no se puede ni se debe naturalizar que las mujeres supervivientes a las violencias machistas sean doblemente victimizadas cuando no directamente violentadas por la institución no

que tienen que tenemos todas las instituciones de aplicar los derechos humanos porque los derechos de las mujeres también

por tanto señalamos hoy que es obligación de las instituciones públicas aplicar la debida diligencia y eso pasa por investigar por acompañar por atender y por reparar de forma integral y específica también a las mujeres pasa señoras y señores por hacer política

debe aprender urgentemente no es una opción no es algo que uno pueda hacer para disimular es una obligación una obligación

en el empleo nos decía la señora artolazabal con su conocida capacidad de encontrar datos para la autocomplacencia que somos referencia comparado con quién me pregunto hoy

en el papel que tienen las mujeres en el acceso al empleo la tasa media de paro de los veintiocho países de la ue es cinco veces más baja que la tasa de paro de las mujeres en euskadi tres de casa cuatro persona empleadas con jornadas a tiempo parcial eran mujeres en dos mil dieciséis dos de cada tres nuevos contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres en la rgi en la prestación complementaria de monoparentalidad

son mujeres las mujeres presentan una peor situación en todos los tipos de pobreza analizados desde dos mil catorce el noventa y dos por ciento de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas son solicitados por mujeres el setenta y cuatro por ciento de las de cuidado de familiares también la renta media son casi diez mil euros más baja en las mujeres que en los hombres

y suponen el cincuenta y seis por ciento de las personas pobres en euskadi

mujeres pero no parece que se vea necesidad de implementar

en fin no hay más que leer con atención las tablas de pobreza del informe de emakunde sobre la evaluación del impacto en función del género de la exclusión social ya ven que no son datos sacados

datos para ver claramente como las mujeres ganamos por goleada

sufrimos mayor pobreza en cualquiera de sus dimensiones y de un modo especialmente grave si atendemos a las mayores de sesenta y cinco o a las que encabezan familias monoparentales

de una manera diferente a la que viene hasta ahora la respuesta propaganda

ayuda a la conciliación que no son más que ayudas económicas que no funcionan y que reproducen roles tradicionales que sacan

la brecha salarial blindan si cabe el techo de cristal y embarran el suelo pegajoso nueve de cada diez ayudas para quedarse en casa a cuidar son para las mujeres

una fantasma ayuda a la corresponsabilidad que no se va a poner en marcha porque no han hecho en el decreto eso sí para hacer publicidad siempre encuentran el momento y ya está esas son las dos grandes novedades del departamento para contribuir a la igualdad va a solucionar esto la situación de las mujeres en euskadi pues nosotros no lo creemos creemos que así no se avanza hacia la igualdad real hacia la igualdad transformadora y no creemos que no escuchen bien

creemos que no porque ni es suficiente ni está bien orientado lo que se hace porque sin perspectiva de género las políticas por acción o por omisión son patriarcales

actuaciones y los valores tradicionales que generan la desigualdad más profundamente arraigada en nuestra sociedad y sin perspectiva de género no hay justicia social para las mujeres es indispensable ampliar la mirada ponerse las gafas moradas y levantar

estén en el centro en el de este departamento especialmente porque atiende a las más vulnerables pero desde luego en el conjunto de este gobierno y para ello

y sus aportaciones como un elemento troncal es indispensable dar un paso adelante y si de verdad se quiere presumir de políticas que haya para ello proponemos que se asuma con responsabilidad y compromiso el ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres revisando todos los planes todas las estrategias todos los protocolos y procedimientos del departamento porque su departamento por acción u omisión voluntaria o involuntariamente de forma sistemática

a las mayores a las pensionistas a las víctimas de violencias machistas a las de aquí y a las de allá están revictimizando están ejerciendo maltrato institucional

y hay que subsanar esto de forma urgente para llevar adelante la revisión se debe realizar una evaluación diagnostica contando con ellas además

de la pobreza y es indispensable partir del conocimiento que ya existe en euskadi para elaborar una estrategia integral azkenik eusko jaurlaritzari

jartzen dugu con políticas patriarcales el bien nunca será común y sin nosotras ni hay justicia social ni hay desarrollo humano

una familia compuesta por cuatro generaciones de mujeres en exclusión social bisabuela abuela madre e hija para cuales la rgi era la única fuente de ingresos con la que contaban para cubrir sus necesidades

de documentación por parte de lanbide la perceptora

la documentación que tenía en ese momento para justificar por qué no la tenía en tiempo y forma y aquí el momento asterix y obelix la primera vez

su dni recientemente y la persona que la atendió le dijo que sin el dni

no iba a aceptarle la documentación que llevaba en la segunda visita acudió con el certificado de policía

y tampoco le cogieron la documentación la tercera vez

aquella vez no le aceptaron la documentación por no llevar el dni

ante las dificultades que encontraba acudió a su trabajadora social que le sugirió concertar una nueva cita en lanbide en aquella ocasión pudo entregar toda la documentación con la que contaba en ese momento pero como en el caso de asterix y obelix ellos lo conseguían a pesar de ello esta persona

por no presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido eta hau adibide bat besterik ez da baina ez dugu ahaztu behar

una buena paella y pasar la aspiradora y limpiar el baño cuánto cuesta cambiarle los pañales a una criatura

cuánto cuesta cuidar de una persona que está enferma y no puede moverse de la cama cuánto vale

cuánto pagarías por evitar una discusión con tu pareja y por tener una hora al día de tiempo propio o de libre disposición

la afirmación de la mayor situación de vulnerabilidad de las mujeres creemos que no podemos ocultar esta realidad

diferentes iniciativas con el objeto de aliar las

creemos que la situación de violencia de genero tiene nombre propio y en este sentido

en la que se produjo un amplio acuerdo y en este acuerdo solicitábamos al gobierno varias cosas entre ellas la remisión del proyecto de ley de erradicación de la violencia contra las mujeres

este proyecto es un compromiso legislativo y además

y es más en un acuerdo parlamentario se quedó acortar

a día de hoy no tenemos noticia de esta normativa en esta cámara y por eso creemos que es necesario instar al gobierno vasco

traiga a esta cámara este importante proyecto de ley berriro eskatu diogu gobernuari ahal den neurrian

eztabaidatzeko por otra parte pedíamos también reforzar los programas que tienen que ver con la prevención sensibilización protección y atención a las mujeres víctimas de violencia de género así como la actualización de los protocolos coincidimos salvo en algunos aspectos de la iniciativa de podemos

la feminización de la pobreza la precariedad en el empleo y la violencia de género pero creo señora guanche que su iniciativa se queda corta o que no es lo amplia que a nosotros nos hubiera gustado

con la desigualdad entre hombres y mujeres como es el tema de la brecha salarial

como es la corresponsabilidad en el ámbito familiar en las tareas domésticas en el cuidado

el propio tema de la conciliación también que recae además especialmente en mujeres que desarrollan las tareas del cuidado de los niños pequeños y también de las personas dependientes en ese sentido creemos que

ha pecado de tener un enfoque un tanto restrictivo y que nosotros creemos que se ha enfocado demasiado desde una perspectiva la iniciativa dejando al margen otras cuestiones que sin duda consideramos relevantes a la hora de abordar este tema todos sabemos que

donde se analiza la pobreza y precariedad su impacto los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión

lo que es la pobreza infantil sobre este punto también hemos debatido en este parlamento en reiteradas ocasiones y hemos alcanzado propuestas concretas para también abordar este fenómeno

se analiza la evolución de las situaciones de pobreza por lugares por edad por nacionalidades por género y también

se trata de abordar los rasgos que tiene la pobreza

que es el tema de la brecha salarial los datos del eurostat y también de otro informe

y las razones que motivan la diferencia

radica que las mujeres ocupan los trabajos peor remunerados que están situados en la órbita del sector servicios cuidados y comercio

ocupan mayores trabajos a tiempo parcial y no se accede a puestos de alta cualificación por lo tanto creo que este es un fenómeno de la suficiente entidad que es necesario abordar y de abordar también cómo no vasco y también tengo que anunciar que nosotros varias de las enmiendas

a abordar la situación de la brecha salarial lamentablemente todavía existente

a la conciliación creo que también las medidas que ha puesto en marcha este ejecutivo

personas en materia de conciliación dejan mucho que desear

en relación también al incremento de anualidades y cuantías se han incumplido compromisos adquiridos

y partidas también que no se han podido ejecutar por la falta de diligencia de este gobierno pero a este tema obviamente me remitiré el próximo viernes en una interpelación

los partidos que apoyan al gobierno que creemos que es un acuerdo positivo y que además se centra en los objetivos que entendemos que tienen que tener una iniciativa de estas características aunque obviamente como le he dicho señora guanche agradecemos que haya traído

cámara señalamos que se cumpla un mandato parlamentario en relación a la adaptación de la normativa de las prestaciones de pago único

se insta al gobierno vasco a continuar adaptando las medidas necesarias para la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres nosotros introdujimos este punto en nuestra enmienda porque creemos que es la cuestión esencial en la que hay que hacer hincapié

pues desaparecerán las discriminaciones que a día de hoy siguen vigentes y

por otra parte instamos al gobierno vasco a seguir desarrollando medidas de discriminación positiva en las políticas de empleo

laboral a las mujeres esta es una cuestión que también preocupa a este grupo y tengo que decir también que en este sentido hemos presentado

a que las mujeres tengan una oportunidad o buscar fórmulas para una mejora de la empleabilidad de las mujeres o dar un empleo a aquellas mujeres que están desocupadas

en las enmiendas también presentadas a estos presupuestos por otra parte también se hace referencia a avanzar en materia de conciliación responsable

cuando señalaba que echaba de menos algunas referencias específicas en la iniciativa propuesta nik uste dut sinatutako

sí gracias presidenta hoy vamos a hablar de políticas de empleo y sociales

así como de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas

y lo digo en positivo porque llevamos treinta años trabajando en esta línea es evidente que a pesar de todo el trabajo realizado hay que seguir avanzando

la igualdad real efectiva porque esta aún no se ha conseguido siendo las mujeres las que más vulnerables son para la exclusión las que más sufren las desigualdades en el marco laboral y sobre las que más recae la conciliación en una sociedad cada vez más envejecida siempre es bueno debatir para avanzar en igualdad

recoge la obligación de todos los poderes públicos de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones siendo además un factor necesario para poder luchar contra la desigualdad aun existente entre

el grupo proponente pone en duda en su iniciativa

como el pacto interinstitucional de apoyo a las familias el plan de inclusión el plan de personas sin hogar el plan de empleo en la misma reforma de la rgi etcétera pone en duda además

y como lo pone en duda quiere poner a examen toda la política del departamento de empleo y políticas sociales y solicita

el elemento troncal de todas las políticas y por ello pide

todos los planes todas las estrategias protocolos y los procedimientos del departamento de empleo da igual si se acaban de aprobar y si han sido consensuados

sean examinados de nuevo efectuándose una evaluación diagnóstico de todos los servicios y prestaciones del departamento donde tienen que participar además

en seis meses realizar un estudio sobre feminización de la pobreza en euskadi y se olvida que para elaborar esos planes se ha dado participación

a los diferentes colectivos afectados de nuevo como nos tienen acostumbrados sus propuestas terminan en realizar informes diagnósticos más estudios hoy nos piden una año para otras cosas para unas cosas seis meses para otra pero dentro de poco nos pueden presentar otra iniciativa donde se reduzca

nunca les parece adecuada la periodicidad de los estudios que se realizan habitualmente y continuamente y si se realiza hoy cada año por poner un ejemplo pedirán que se realice en menos y el grupo eh bildu ha firmado la enmienda transaccional donde se mantiene esta

original presentada por el grupo elkarrekin podemos y desde luego mi grupo parlamentario los socialistas vascos no estamos de acuerdo con la iniciativa presentada por las razones que voy a exponer a continuación porque

se ha incluido la perspectiva de género y se incluyen medidas para conseguir la igualdad real en nuestra sociedad aunque haya que seguir insistiendo en ellas

es aplicado por los diferentes departamentos del gobierno y se cuenta con recursos presupuestarios para ello las mujeres estamos de acuerdo

y cuentan con mayores dificultades para desarrollar su carrera profesional dado que sigue recayendo sobre ellas fundamentalmente la conciliación familiar las mujeres son el colectivo que más ha sufrido los recortes

y la reforma laboral del dos mil doce gracias al grupo parlamentario socialista y así se acordó con el grupo nacionalista vasco durante los años en crisis de las crisis no se hicieron recortes en políticas de igualdad ni de violencia de género en comunidad autónoma y eso es importante y esa línea no se ha seguido en otros ámbitos como en los presupuestos estatal es evidente sin embargo que hemos ido avanzando y que la tasa de ocupación de las mujeres en los últimos veinticinco años se ha incrementado y a pasar en un diecisiete coma dos por ciento pasando del veintisiete coma uno al cuarenta y cuatro coma tres y en la tasa de parcialidad ha bajado en euskadi

que en el cuarto trimestre del dos mil diecisiete y ocho coma cuatro puntos menos que en el cuarto trimestre del dos mil dieciséis

a políticas que se han puesto en marcha para conseguirlo desde el departamento de trabajo y justicia

el número de contratos regularizados a requerimiento de la inspección de trabajo del país vasco en el desarrollo ordinario de las campañas en materia de fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial

de los cuales tres mil trescientos diecinueve afectan a las mujeres y dos mil ochocientos cuatro afectan a los hombres si a esto se le unen

contratos regularizados por las empresas en euskadi como consecuencia de los dos planes de choque previstos por el plan director de la inspección de trabajo iniciado como todos sabemos en agosto del dos mil dieciocho tenemos globalmente

o regularizados se ha puesto en marcha un plan de choque contra la brecha salarial desde diferentes departamentos donde se incluyen programas de ayudas para el diagnóstico

la acreditación y certificación de empresas en el ámbito de conciliación corresponsable

campañas desde la inspección de trabajo específicas para luchar contra la brecha salarial se siguen incentivando la presencia de mujeres en los sectores que se encuentran insuficientemente representados

dentro del proyecto de presupuestos diecinueve millónes de euros para financiación de los permisos a progenitores

de colectivos en desventaja donde están esas mujeres uno millón de euros destinados a proyectos singulares que generan opciones de empleo señora guanche ustedes vienen aquí

pero no dan apoyo a unos presupuestos donde se recogen partidas para poder llevar a cabo

anteriores e intentan lavar su conciencia así pero para nosotros lo que verdaderamente cuenta es poner en marcha políticas que vayan ahondando

se están dando pasos constantes para avanzar en esas políticas de igualdad y en la corresponsabilidad en los cuidados en la parentalidad positiva tan importantes para avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que hay cuestiones que se deben mejorar y que hay que dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el parlamento el once de mayo del dos mil diecisiete con el fin

único a la modificación de la ley uno barra dos mil cuatro siempre se puede mejorar pero no se de que se van haciendo muchas cosas y se va avanzando en esa línea

el grupo nacionalista vasco mi grupo el grupo socialista y el grupo popular desde luego agradezco el esfuerzo realizado por el grupo popular para poder llegar el acuerdo porque creemos que se ajusta mucho más a lo que hay que seguir realizando para avanzar en la línea correcta y dentro del primer punto se incluye que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a dar cumplimiento al acuerdo de la cámara de once de mayo de dos mil diecisiete para que se continúen adoptando las medidas necesarias para la consecución de una igualdad real y efectiva y se sigan desarrollando medidas de discriminación positiva en las políticas de empleo que desarrollen con el objetivo de aumentar

de las mujeres y también se insta a que el parlamento vasco a que el parlamento vasco inste al gobierno vasco

compartida tanto por hombres como por mujeres porque se está
trabajando en ello y se va a seguir trabajando en ello nada más y muchas gracias eskerrik asko sanchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

remar juntos en la misma dirección avanzar tenemos camino por hacer pero es justo reconocer que hemos avanzado que estamos mejor de lo que estuvieron nuestras amamas y de lo que pudieron imaginar las generaciones anteriores y sí señora guanche asiente y lo ha reconocido también en su primera intervención pero después su discurso la verdad

o las manifestaciones que hace son contrarias a ello pero no nos conformamos

tarea nada fácil en la que es necesaria la implicación de todos y todas en la que es imprescindible la implicación de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto la igualdad entre mujeres y hombres requiere el compromiso compartido los grupos políticos a nuestro juicio es un tema sumamente importante que debiera de quedar fuera del rifirrafe político que requiere consensos trabajo en común no se trata de ver quién presenta más iniciativas relacionadas con este tema de intentar

pretendiendo ser los únicos que trabajan por su consecución

nadie sobra a la hora de trabajar por la obtención de la igualdad todos y todas debemos aportar la justificación de la moción dice

a la feminización de la pobreza y a las violencias machistas

gaitzespena zuen diskurtsoak errealitatetik aldenduta daude faltan alternativas reales y específicas otra de sus críticas de la interpelación

reales y específicas de elkarrekin podemos más allá de la crítica feroz sailaren politikak patriarkalak eta aurrekontuak neoliberalak direla diozue

ezkorrak kritika negatibo gordinak proposamen gabekoak la enmienda que presentamos es clara reconoce que se está trabajando por la igualdad y se insta al gobierno vasco a que continúe aplicando medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso al mercado laboral de las mujeres porque evidentemente es una realidad que todos y todas reconocemos y algo debe de estar haciendo bien el departamento señora guanche a pesar de sus discursos

así lo reflejan en noviembre el paro ha descendido y el perfil de las personas paradas con mejor evolución se corresponde

mujeres de entre veinticinco a treinta y cuatro años el segundo punto insta al gobierno vasco a continuar avanzando en materias de conciliación corresponsable

también es necesario e imprescindible para alcanzar la igualdad que todas defendemos y por último se insta al congreso de los diputados a que hagan un análisis de las ayudas concedidas a mujeres

que se está planteando la modificación de la ley que las regula para adecuarla a la realidad social del momento en euskadi emakunde ha decidido promover

bien reformando la ley de igualdad vigente o por medio de una nueva ley de erradicación de la violencia de género como bien saben y además se ha mencionado

porque además ha sido tratado en varias ocasiones en este parlamento

portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hablado del plan de choque de brecha salarial también otra de las

a nuestro juicio es una vez más reflejo de que al gobierno le preocupa y ocupa la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres trabajando todos los días por mejorar dicho desequilibrio y sin renunciar a erradicarlo como no podía ser

y finalizo como he empezado apelando al trabajo en común de todos y todas para la consecución de la igualdad en el estado español también así se ha entendido

que recoge doscientos trece medidas de las cuales algunas implican la modificación de la ley uno barra dos mil cuatro y en concreto a la ayuda de pago único por ello entendemos más adecuado esperar a dicha modificación de la legislación para poder proceder a adecuarla aquí en euskadi alderdi popularrarekin sinatutako erdibidekoak

la primera perdonar si me caliento yo la verdad es que quería salir tranquila pero es que los puntos de vista en la medida en que vas sabiendo cosas a veces hacen que

lo segundo que quiero hacer es agradecer a eh bildu las aportaciones que ha hecho a nuestra enmienda y

yo he acompañado durante mucho tiempo muchas mujeres en la pobreza en la violencia machista y desde ese acompañamiento veo trabas veo inhumanidad veo un peloteo sistemático de seres humanos entre unas instituciones u otras

veo que más allá de los planes bonitos y de lo que aquí hablamos hay una realidad que está dejando a las mujeres al margen y eso

considerando que aquí la labor de impulso al gobierno también se puede tener en cuenta aunque van más allá de los partidos que le soportan

señora garrido para nosotras esta proposición quería dar un paso más allá de la concepción de la violencia machista

hecho una enmienda de adición o hubiéramos comentado los temas que echaba en falta

es una pena es una pena nosotras entendemos que el enfoque de las políticas sociales que se dan ahora mismo en el departamento de empleo y política sociales son políticas profundamente patriarcales y lo siento si a usted le parece un mantra pero es que a nosotros nos parece el adjetivo más adecuado es necesario nombrarlo es necesario ir más allá de lo que se dice que se hace

con una perspectiva de género profunda si no miramos a ese

a veces no nos damos cuenta de que estamos dejando a gente por el camino señora sánchez le cuento que si el problema era de plazos también lo podríamos haber hablado solo que luego cuando la gente no responde ni siquiera los correos pues resulta difícil

le explico en el pacto de familia que firmaron ustedes con agentes sociales sobre todo con confebask

hay un informe yo no he dicho que no lo haya hay un informe de evaluación del impacto de género y de hecho es el único que he conseguido encontrar que lo que dice es lo que he leído al inicio de mi intervención es decir que la perspectiva de género se está enfocando como una medida parcial y no como un elemento transversal que es lo que debería

no lo he encontrado he preguntado he pedido no está o no es accesible no importa lo voy a volver a pedir ya he informado en esta tribuna en mi primera intervención que voy a pedir todas entonces veremos si me estoy equivocando entonces lo admitiré no tengo ningún problema por supuesto hablemos de la reforma

hablemos porque son ustedes quienes han incluido el concepto de

que sea libre para criticar un concepto que está ampliamente superado desde hace muchísimo tiempo y estese tranquila porque mi conciencia diciendo que no a estos presupuestos que también considero que no dan soluciones

la próxima no sé si yo me tengo que explicar mejor o hay que escuchar mejor yo sí he dicho que no es que no se haga nada y que no es que nada valga es que nosotras consideramos que no hay suficiente y que no está bien enfocado y entonces traemos iniciativas de contribuir a un enfoque diferente lo que pasa es que molesta en general molesta mucho que se diga que las cosas no se hacen perfecto

y demostrado sistemáticamente en esta cámara creo que semana a semana por ello no nos vamos a oponer a su iniciativa vamos a abstenernos nos vamos a abstener porque en el primer punto

en el segundo y en el tercer punto consideramos que eso no sirve para cambiar nada es continuar lo que se está haciendo y en el cuarto punto

porque lo hemos leído en el informe de emakunde aparte de por lo que nosotras podamos pensar por nosotras mismas que la igualdad y la corresponsabilidad es algo que va más allá del ámbito de la familia que es una de las grandes concepciones donde tenemos

nos abstenemos porque consideramos que no es suficiente y que no aporta casi nada nuevo pero seguiremos proponiendo lo que consideremos a bien para mejorar

no es para sacarnos una foto pero en aras al consenso no se pueden secuestrar posiciones políticas estoy segura de que tendremos tiempo para trabajar y poner concretamente cuáles son nuestras alternativas pero desde luego lo hemos dicho reiteradamente y ya termino señora presidenta más recursos y más diálogo de verdad del que se escucha y luego haya una

menos convencimiento de que todo lo que se hace es perfecto besterik ez mila esker eskerrik asko guanche

que nos hemos quedado con la nuestra bueno beste proposamen bat egon da mahai gainean non guztiak

geneuzkan eta horren arabera akordio bat sinatu dugu por otra parte señora guanche la pasada semana esta parlamentaria trajo

iniciativa específica en la que se llegó a un amplio acuerdo en algunos puntos en los términos de otros acuerdos anteriores y sobre algunos aspectos concretos porque este gobierno en relación a la remisión del proyecto de ley de violencia de género hay que decir que no estoy cumpliendo los deberes pero lamentablemente ustedes no estuvieron en ese acuerdo

yo no sé si porque en ese caso los proponentes no son ustedes y ustedes que intentan en esta cámara pleno tras pleno que me parece muy bien

ciertos temas en esas ansias de querer hacer cosas por ser un partido nuevo que está muy bien

cuando las iniciativas provienen de otros grupos y creo que esta vez a usted también le ha pasado lo mismo le ha pasado lo mismo y desde su óptica ha planteado una iniciativa pero creo que su iniciativa

desde otros muchos aspectos que es lo que hemos tratado del grupo popular hacer con nuestra enmienda y al final nuestra posiciones y postulados recogidos en ese enmienda

yo creo que todos los grupos parlamentarios de esta cámara estamos de acuerdo en que desde todos los grupos tenemos que trabajar por la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres todos tenemos que aportar nuestros granitos de arena para ir todos juntos en ese camino que es el que le interesa

de ningún partido es algo de todos y por el que tenemos que luchar absolutamente todos y no es una carrera de venir aquí a decir quién hace más quién hace menos porque

los partidos políticos que llevamos más tiempo en política evidentemente hemos tenido más tiempo para hacer

evidentemente pero yo creo que lo importante es ir trabajando en esa línea todos la señora etxebarrieta le ha extrañado de que yo hiciera referencia a políticas que se han llevado a cabo

pero si estamos hablando de que estamos realizando políticas de que

de que hay problemas de temporalidad y es importante reducir intentar luchar contra el fraude en esa temporalidad y contra la y en la parcialidad evidentemente hay que poner en valor

por este gobierno vasco desde el departamento de trabajo y justicia y que además han tenido importantes resultados porque son positivos y es importante ponerlos en valor entonces no entiendo por qué le extraña que ustedes han estado hablando de temporalidad parcialidad y de los problemas

para conseguir reducir esa situación con lo cual es muy normal que se hable de ello y además se pongan en valor esos buenos resultados nosotros evidentemente desde un primer momento hemos considerado que era

una transacción y la hemos efectuado con el partido popular porque lo veíamos más centrado las en lo que había que en las políticas que había que seguir realizando no estábamos de acuerdo con la elaboración en la necesidad de tener que elaborar ese estudio diagnóstico y por tanto pues no estábamos de acuerdo en firmar enmienda transaccional no pasa nada cada partido puede tener sus planteamientos considerar si puede ser mejor o peor y si no estamos de acuerdo

en otras ocasiones en otras materias y hemos buscado la transacción que más era acorde

que teníamos que realizar y eso es lo que hemos llevado a cabo porque ustedes también en su

querían efectuar un estudio diagnóstico de todos los planes de todas las políticas de todos los protocolos pero cuando han puesto ejemplos de situaciones que les parecían que había que corregir no han hablado de puntos de esos planes de esas políticas de esos protocolos han puesto ejemplos de lanbide o de renta de garantía de ingresos con lo cual no sé exactamente bien

y luego directamente dicen bueno vamos a hacer el estudio diagnóstico nosotros no estábamos de acuerdo porque no tenía mucho sentido y por tanto eso es lo que hemos defendido y por otro lado también ponían en duda de que por ejemplo

de apoyo a las familias se habla de natalidad pues eso puede ser que estemos hablando o

patriarcales hombre si estamos hablando de un plan de apoyo a las familias evidentemente se recogen cuestiones que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres pero también tendrás que hablar

dentro de nuestra sociedad en estos momentos por las dificultades que tienen los jóvenes por una serie de políticas también que se tienen que llevar a cabo para aquellas familias

para poder salir adelante porque también se tiene en cuenta y son datos que en el ámbito de la pobreza los mayores afectados son las familias

que tengan que apoyar en esa línea de todas las políticas son necesarias hay que hacer políticas a favor de la igualdad

políticas de apoyo a las familias y todas son con perfectamente compatibles y a todas hay que atender porque son y recogen situaciones que afectan a toda la ciudadanía y que hay que efectuar políticas que intenten paliar las situaciones

queda trabajo por hacer mucho trabajo y en eso yo creo que

que nos queda trabajo por avanzar reconociendo también

que parte del camino hemos hecho quizá más lento quizá menos de lo que nos gustaría

pero es justo reconocer que se ha hecho pero lo que negamos

de falta de voluntad política de falta de sensibilidad de inhumanidad de

no es cierto y esos discursos desde luego desde nuestro punto de vista en nada ayudan a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres porque desde luego nosotros lo que entendemos es

acuerdo escucha consenso avanzar pero

no ayudan ya se lo hemos dicho en más de una ocasión pero y el tono creo que eso no ayuda porque si de verdad está buscando esa igualdad creo que el decir que el gobierno no está haciendo nada o que es inhumano o que las políticas que plantea que son el maltrato institucional pues negamos la mayor y así es difícil

y hablando claro que es importante la perspectiva de género totalmente de acuerdo y creo que también ha quedado claro que todos los grupos

entiende que es importante creemos

discursos críticas y presentar iniciativas concretas y reales efectivas y con posibilidades de llevarlas a cabo pero tampoco creemos que es un problema que solo se está dando en euskadi que antes le he hecho una pregunta porque evidentemente en otros pueblos y hacía mención la señora

políticos o en otras comunidades autónomas en otros estados e incluso a los cuales miramos también existen desigualdades

por lo tanto pues no es una cuestión de que se apruebe un plan de que se meta

posible llevar a práctica lo que se pone respecto a bildu aitortu behar dizut ez naizela bat ere komikizalea

han venido a euskadi así que estamos contentos un gran esfuerzo eta

un gran esfuerzo y encima han venido a euskadi encima han venido a euskadi así que estamos contentos

a decirnos que no hay seguridad social han venido a euskadi a decirnos que no hay seguridad social y si no hay seguridad social hay inseguridad social es bastante lógico eta uste dugu

beste gauza batzuen artean considera que la inmediata transferencia de las competencias en materia de seguridad social a la comunidad autónoma de euskadi es una condición imprescindible para mejorar la situación de las personas pensionistas ezinbestekotasuna

orain ez dela urgentea gizarte segurantzaren transferentzia egitea las partes comparten debido a la complejidad de la materia que la inclusión de la seguridad social en el calendario

en su texto dice que es imprescindible entonces guk galdetzen duguna hori da no es urgente mejorar por ejemplo la vida

mediante la rgi solamente se atiende a quince mil de ellas esa es la cuestión hori jarri dugu

horren ezinbestekotasuna porque es prioritario tal y como se recoge en la enmienda transaccional firmada por pnv psoe

hain urgentea todos coincidimos en que es prioritario porque no tener seguridad social significa no poder incidir en un tercio

sobre nuestras contingencias en materia económica significa perder el control de nuestros activos públicos y en definitiva significa

que son nuestros no poder contar con

estruktural baten aurrean nos encontramos ante un problema estructural

tenemos a un partido socialista que está en el ejecutivo vasco y está en el ejecutivo

no vamos a tolerar el traspaso de prisiones

no vamos a tolerar entonces no va haber presiones

porque pablo casado lo ha dicho porque pablo casado lo ha dicho ese es el problema estructural que enfrentamos

partidistas de ciertos partidos políticos españoles están por encima de la ley están por encima de la ley una ley orgánica

pero los intereses partidistas repito de ciertos partidos políticos españoles

hay que poner pie en pared eta guk esaten dugu de acuerdo hay que poner pie en pared

aquí se comparte programa se comparte programa se comparte ciento cincuenta y cinco

al menor guiño empieza a hablar del ciento cincuenta y cinco se comparte programa ciento cincuenta y cinco recentralización y si nos apuran o si apuramos un poco más incluso de recuperar sanidad y educación

problema estructural se dice por eso y segunda pregunta qué se quiere decir

pero qué se quiere decir qué ese el pie en pared político

estamos en tiempos de descifrar políticamente

segunda pregunta que le lanzamos al partido nacionalista vasco para euskal herria bildu

articular mayorías sociales institucionales en base a un proyecto de país en base a un proyecto de país

se acabó lo que se daba entonces este parlamento hace una lectura en base a ese problema repito estructural

no hay tercera vía no hay tercera vía el federalismo ha muerto antes que nacer antes de nacer

qué es lo que hacemos ante esta situación qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación eta guk uste dugu lehenik eta behin auzitan

y en este sentido seguimos pensando que es necesario ir todavía un paso más allá y lograr competencias que permitan avanzar en el autogobierno en temas económicos y en temas sociales

una vez más y décimos sí a la posibilidad de gestionar más competencias ahondando en nuestro

autogobierno pero décimos que más importante de es lo que gestionamos es bajo qué proyecto político queremos llevarlas a cabo y por eso trabajaremos para que dichas competencias no sean meras acumulaciones de poder en euskadi sino que realmente contribuyan a mejorar la vida de tantas y tantas ciudadanas vascas porque de qué sirven las competencias si no las dotamos de contenido que realmente dé soluciones a la ciudadanía

ayer mismo tuvimos el pleno de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos

si seguimos dando palos de ciego con una política que ha demostrado ser fallida

en permitir echar el cerrojazo a la naval por eso lo que pensamos es creo que debemos pensar en cómo vamos a dotar de contenidos dichas competencias

pensemos en cómo ahondar en el autogobierno para crear un verdadero proyecto de país y construir una euskadi plural en la que nadie sobre por pensar o sentirse diferente y en la que la igualdad los derechos sociales el empleo y el feminismo sean los pilares centrales

y para poder realizar dicho proyecto para poder trazar las líneas tal y como decíamos antes

se haya reunido y creemos que es necesario que se den pasos para un desarrollo

de la ciudadanía vasca por ello entendemos que es prioritario defender un sistema de previsión social universal suficiente y cómo no público eso es para nosotros lo prioritario que el sistema sea público universal y de calidad por qué pues porque

y solo este el que realmente es garante de una vida digna para el conjunto de la ciudadanía para el total de la ciudadanía vasca y por ello en nuestra enmienda planteábamos claramente

que queremos un sistema público solidario y de reparto porque existe un debate ideológico profundo que no se da solo en euskadi o que no se da solo en españa

como el que tenemos actualmente que sin duda es muy mejorable y que necesita de reformas para garantizar mayores ingresos y elevar las prestaciones

basado en un sistema mixto que mantenga las pensiones y otras coberturas públicas en niveles insuficientes para que tengan que ser completadas con planes privados para poder tener una cobertura digna para que la ciudadanía pueda tener una cobertura digna no y algo que además nosotros entendemos que es insolidario e injusto pero además dejaría fuera de la protección

y por eso no compartimos las recientes declaraciones del señor azpiazu en la que denunciaba la apuesta del gobierno vasco por premiar fiscalmente a las epsv

para modelos de pensiones privados a los que no pueden acceder las personas humildes las personas sobre todo las más vulnerables

el cuestionamiento que algunos hacen sobre la viabilidad a sistemas del sistema público de pensiones para ofrecer ayudas a sistemas privados

significa asegurar una vida digna a los vascos y las vascas y eso

un sistema de previsión social público y universal un sistema cuyas prestaciones públicas sean suficientes para una vida digna y que no obligue a nadie a contratar complementos privados y por eso

y así lo venimos defendiendo lo defendimos en este parlamento cada vez que debatimos sobre el sistema de seguridad social y décimos transferencias sí pero sobre todo queremos por eso entendemos que debe darse el abordaje de la transferencia de la seguridad social y que esta debe realizarse con el máximo rigor porque la seguridad social afecta a los únicos ingresos de decenas de miles de personas mayores y trabajadores en diferentes situaciones que cubre la seguridad social y porque pese

esta transferencia sea una cuestión de cierta complejidad que no se resuelve sin duda con ocurrencias no debe ser excusa para no abordarse y este debate que necesariamente debe ser sereno pues por responsabilidad tanto

atascado entre reproches y como decía pues dada la complejidad de la transferencia de la seguridad social entendemos que cabe instar a las instituciones de la comisión mixta de transferencias a que concrete un calendario específico para el cumplimiento sin más demora del artículo dieciocho punto dos y disposición transitoria quinta

pero sin embargo entendemos que no cabe engañar a tantas y tantas personas pensionistas que llevan más de un año

décimos que la solución al problema de las sostenibilidad de las pensiones de la seguridad social en su conjunto pues no pasa por si se materializa o no la transferencia

entendemos que la solución pasa por cómo se gestione porqué modelo de seguridad social

uno pensado para cubrir a todas las personas o uno asistencial para cubrir solo los mínimos y la solución al problema de la sostenibilidad de las pensiones pasa por

instalado en el empleo de nuestro país para apostar por un modelo de valor agregado donde el empleo existente sea estable y de calidad

en los últimos años como el de lanbide pues donde se ve cómo se ve claramente cómo las transferencias realizadas

político de corte altamente social pues pueden tener consecuencias nefastas para la ciudadanía de euskadi y en debates anteriores no llegamos a acuerdos en esta materia pues porque solo se hablaba de la transferencia en sí no del modelo

muy positivo que esta vez hayamos conseguido introducir en la enmienda transaccional

en nuestra enmienda realizada un modelo que garantice desde lo público

privadas con el discurso del miedo y acabo reafirmando el valor de la transacción acordada valoramos positivamente la reunión de la comisión mixta de transferencias tras siete años de bloqueo aunque somos conscientes

y precisamente por eso instamos a la realización de un calendario para la transferencia de la seguridad social el cumplimiento de la actual estatuto de gernika y lo que es más importante para nosotros como decía

se defiende un sistema de previsión social público universal y que asegure una vida digna al total de la ciudadanía y para finalizar pues me gustaría manifestar que para

el autogobierno debe ser una herramienta para gestionarlo colectivo para gestionar lo de todos lo público al servicio de una sociedad vasca justa e igualitaria y por eso creemos que no debe ser para implantar modelos injustos y desiguales

gracias presidenta bien el grupo socialista va a volver a defender en esta sesión

para la resolución de los problemas políticos para llegar a puntos de encuentro desde las diferencias para haber desarrollado nuestro autogobierno en el pasado

para que sea un éxito para el futuro es una apuesta inequívoca y constatable por parte del socialismos vasco cuando hemos estado en el gobierno y en la oposición y es una apuesta inequívoca del psoe que cuando ha estado en los gobiernos de españa ha propiciado el cumplimiento más amplio que se haya dado en nuestro estatuto

ha sido leal valedor de los compromisos adquiridos por gobiernos dirigidos por otros partidos o en españa si los acuerdos del veintiséis de noviembre en la comisión mixta de transferencias los hubiera propiciado el gobierno de rajoy diríamos lo mismo sobre su valor no ya el de estas tres materias en concreto que están acordadas sino porque se hubiera recuperado el imprescindible clima de lealtad y colaboración entre las instituciones y de hecho con el acuerdo sobre el concierto así lo hicimos

y lo hizo el psoe entonces en la oposición como siempre ha ratificado en el congreso estos acuerdos pero con las materias

y con las competencias netas que recogen nuestro estatuto no había sido posible

pero no había sido posible hacer un hueco en la agenda técnica la que desbroza el camino de las dificultades ni hacerse un hueco en la agenda política que es la que desbroza el camino de los acuerdos

que quienes lo propiciaron debieran saber leer en el que en el plazo de un solo mes uno solo

dos decisiones nítidas primera un acuerdo que desbloqueara los asuntos que estaban en los tribunales por el empecinamiento que tenía el anterior gobierno

y ese primer acuerdo es el que ha permitido entre otras cosas que los empleados públicos vascos empiecen a recuperar parte de sus derechos salariales y un acuerdo para que una comisión trabajará

que el gobierno vasco aprobó hace un año y que comenzará por aquellas donde el constitucional se había pronunciado ya de forma favorable

y riguroso de neto compromiso político donde las discrepancias técnicas y económicas se han corregido porque existía la voluntad clara política por ambas partes

el resultado es la reapertura de un camino que debe continuar de forma rigurosa leal

ni a uno mismo ni a los ciudadanos y sin una sola renuncia de ni una sola competencia de las recogidas en el estatuto es lo que tiene la bilateralidad esa palabra que tanto se carga de simbolismo pero que ya está prevista en nuestro propio estatuto precisamente para hacer posible eso de lo que estamos hablando hoy

el cupo derivado del concierto otro mecanismo que se sustenta en esa bilateralidad que exige el acuerdo para hacer las valoraciones económicas pertinentes que es lo que defendíamos y lo defendemos quien parece no lo ha entendido ha sido bildu

que a una preocupación real por los problemas de la seguridad social porque por cierto señor urruzuno eso de que no hay seguridad social en euskadi no es verdad

estatal que garantiza las pensiones de los ciudadanos qué no es todo lo completo

qué hay que mejorarlo por supuesto pero hay seguridad social afortunadamente existe una caja solidaria entre generaciones y entre territorios que funciona

y la contraria algo por otra parte bastante habitual en ese grupo porque en el primer punto pide la transferencia inmediata de la gestión de la seguridad social y en el segundo dice

pide lo que hay y pide a la vez lo que no hay no y después yo quiero insistirle es que a nosotros nos gusta el sistema público estatal y es nuestra prioridad política ese es el que hay que mejorar el que hay que reforzar y el que hay que garantizar su calidad y su disponibilidad en el futuro

que se han planteado aquí desde los vasco vasco de txapela

para pobres y ese no es nuestro modelo nuestro modelo es el otro pero esta propuesta nos ofrece una buena ocasión para recordar lo conveniente que sería para todos

lo conveniente que ha sido y que está siendo la vía del diálogo

y el acuerdo y lo peligroso que sería buscar un atajo lo conveniente que sería abonar bien este terreno en el que estamos pisando ahora que lo hicieran todas las fuerzas

y también quienes no lo hicieron porque en estos últimos días hemos visto una alarma entre muchos porque haya quien

abogando por el fin de lo que tenemos es verdad que se ha dado esa dinámica

porque los valores y principios que nos han hecho progresar propiciando una cohesión social muy mejorable pero como no la hemos tenido nunca se han construido desde el acuerdo y la lealtad

de lo que se podía aprovechar y así con ese esfuerzo se ha hecho la sanidad la educación pública el sistema de protección social los avances en igualdad nuestras libertades

y del euskera siempre en torno a grandes consensos

desde los dos extremos que se retroalimentan a sí mismos porque se justifican en la fundamental en el desprecio a ese recorrido que se ha hecho en el marco constitucional

y a mí cuando usted habla de problema estructural pues yo tengo que decirle que problema estructural lo tienen ustedes porque a mí sorprende que ahora se quieran convertir ustedes en valedores del pacto estatutario

y no dialécticamente abalando determinadas actitudes que desde la violencia impulsaban no quiero calificarlos actuaciones y sucesos nada recomendables por ir en contra precisamente del estatuto porque quiero recordarles un tema no me gusta hablar de estos temas porque lo tienen superado pero cuando más mató eta fue precisamente a raíz de la aprobación del estatuto de gernika

con el marco en aquel momento es verdad que estamos en otro tiempo pero creo que todos tenemos que hacernos mirar el tema ustedes siguen teniendo un problema estructural ustedes dicen que quieren cambiar pero no lo acaban de hacer ustedes dicen que se han transformado pero simplemente se han trasvertido de momento

pero no acaban de cuajarlo ustedes quieren jugar a la lealtad institucional y a la utilidad política veremos en qué queda ese amago que han hecho de cara a los presupuestos pero de momento les cuesta

determinadas cosas y el grupo socialista cree que es un momento más oportuno que nunca para la reflexión por parte de todos los que estamos aquí para saber qué podemos hacer

y qué vamos a hacer para asegurarlo y tenemos la convicción de que lo que más nos convendría a todos

pero sobre todo a los ciudadanos a sus derechos y libertades sería afianzar este tiempo abierto para el diálogo la negociación el acuerdo y la lealtad institucional y aquí hay responsabilidades de los dos gobiernos que hasta ahora han demostrado voluntad

y a todos los agentes sociales y por eso nos sentimos reconocidos y satisfechos de esta enmienda hemos pactado con el partido nacionalista y con podemos porque creo

que es la convocatoria de la comisión mixta de transferencias se hace una apuesta inequívoca por el estado de bienestar y por la defensa de lo público y se vuelve a reiterar nuestro compromiso

textualmente el acuerdo de gobierno que tenemos suscrito dentro de lo que recoge
nuestro actual estatuto de gernika eskerrik asko pastor jauna

lan ikuskaritzaren eskumena pendiente ere políticas activas de empleoren osagarri bezala edo instituto nazional de la seguridad social bezala ezagutzen den hori edo baita ere instituto social de la marina

instar al gobierno vasco a incluir con carácter prioritario

de las competencias en materia de seguridad social

inspección de trabajo y seguridad social para culminar la transferencia de políticas activas de empleo instituto nacional de la seguridad social instituto social de la marina régimen económico de la seguridad social

señor urruzuno sí hay seguridad social en el país vasco a pesar de ustedes y a pesar de en fin

que no les ha gustado nunca que haya pero hay y desde hace muchos años

yo no sé si el señor azpiazu dijo que era imprescindible la transferencia para mejorar las pensiones porque el señor azpiazu sabe perfectamente

no da para incrementar ninguna pensión por lo tanto no sé si lo dijo a mí me extrañaría un poco que lo haya dicho

pero bueno si lo ha dicho él él sabrá por qué lo ha dicho pero se equivoca

gracias al sistema nacional que lleva gestionando y garantizando

años pese a ser deficitario en el país vasco desde antes de la crisis y desde antes que se incrementará el paro los vascos cobren su pensión gracias a ese sistema nacional de solidaridad que tenemos porque si no

esa pensión y eso sin contar a todos esos vascos que deciden en fin se jubilan cobran la pensión y se van a benidorm porque incrementaría mucho más ese déficit que tenemos los vascos

como el resto de los españoles y como no podía ser de otra forma y lo que yo no le puedo admitir es que usted nos diga que no podemos contar con los ocho mil millónes que son nuestros pero cómo que son suyos ni suyos ni míos no no son nuestros señor urruzuno

es la garantía de que puedan cobrar su pensión yo no sé aquí quienes cotizan y cuánto cotizan o qué dejan de cotizar pero cómo que son nuestros oiga y los once mil de déficit

los pagamos nosotros con qué no dígame usted con qué

del último año tres mil millónes de euros de déficit de quién son

a defender el estatuto y al cumplimiento del estatuto autonomía de gernika

dentro la política esta de ver cómo metemos el dedo en el ojo entre partidos nacionalistas está muy bien pero vamos usted comprenderá

usted nos decía el peligro estructural oiga ustedes son su partido son su grupo son

porque han atentado contra ella desde el principio y así y todo fíjese la democracia española ha sobrevivido

no conozco a nadie que esté en contra y

y lo que habrá que hacer es poner las condiciones para que además dure muchos años y habrá que reformarlo pero bueno no es el momento

de las obligaciones y de la defensa de las competencias propias del gobierno de españa

yo le tendré que decir que para nosotros es una muy mala noticia eso no es desbloquear eso es hacer dejación de sus funciones y competencias

y transferencias muy bien ya veremos al señor egibar le voy a dar la razón en una cosa

que se va aprobar aquí va a durar más que el gobierno de españa ahí usted y yo vamos a coincidir

y va a durar más que el gobierno de españa porque en la transacción que ustedes han firmado en el primer párrafo dice se desbloquean siete años casualmente los siete años que lleva el señor urkullu de presidente del gobierno vasco

la anterior vez cuando el señor ibarretxe dejo de ser lehendakari le tengo que recordar que el partido nacionalista vasco no quería recibir competencias y transferencias de competencias hablamos de las políticas activas señor egibar que hubo que cambiar el gobierno vasco y con lehendakari socialista entonces ya sí se pudo negociar el traspaso de las políticas activas

diez años después de que la última comunidad autónoma ya las había recibido porque ustedes se negaban porque este es un tema de lealtad

y no y ustedes venden como incumplimiento del estatuto de gernika como excusa política está muy bien

y cuando hablamos de esta materia señor pastor de seguridad social nosotros hemos planteado ya el año pasado por estas fechas hace

como dice la constitución y como tiene ya interpretado el tribunal constitucional eso es lo legal eso es el estatuto ese el cumplimiento del estatuto o el señor egibar y el partido nacionalista vasco es intérprete único

no parece muy democrático esa postura verdad y en los sistemas democráticos cuando alguien discrepa

ni el partido popular había gobernado ni se esperaba que gobernarse del año noventa y cinco

lehendakari decía que eso es mercancía averiada oiga esa es la mercancía que está pactada en el estatuto

que se incumple el estatuto lo cual no es cierto ustedes son los que no quieren cumplirlo dicen no nos gusta este estatuto queremos cambiarlo queremos esta competencia así por qué no lo dicen pero luego nos dice también cómo piensa financiar ese déficit de pensiones

que por cierto en el primer punto interpretado como yo le digo que se

el segundo párrafo que ponen ustedes hombre que el sistema de garantice el bienestar de todos los ciudadanos la seguridad social no oiga de los cotizantes no es que estamos siempre aquí mezclando de los ciudadanos que cotizan eso

si usted señor bollain o el partido nacionalista vasco o el partido socialista lo que nos están planteando es que el sistema de seguridad social y las pensiones tiene que ser una especie de rgi nacional pues le diré que no porque además

y lo sabemos todos yo señor egibar si quiere

la misma que hemos presentado hace un año hace dos años hace tres años pero que el partido nacionalista vasco haya votado en este parlamento en contra de recibir la transferencia de la seguridad social como dice la constitución y el estatuto que por cierto se les olvida señor pastor porque ustedes firmaron con nosotros eso hace dos años se les olvida poner en el tercer párrafo

que dice que es competencia exclusiva del estado la gestión de la seguridad social

el tribunal constitucional cómo se resuelve eso que por cierto en la propia ficha del gobierno vasco se citan estas sentencias se citan estas sentencias y cuando nos habla del paro también le dicen en las fichas del gobierno vasco que está fuera del sistema de seguridad social y que no es gestión del sistema de seguridad y tiene una sentencia del tribunal

todo el rato y repetir las mismas cosas muchas veces esto ya se lo inventó goebbels hace mucho tiempo pero

que este es un tema de lealtad institucional y constitucional y claro cuando nos vienen aquí

y ustedes también pero no porque lo que quieren es otra cosa y acaban de pactar demoler el estatuto y la constitución

hay que diferencias planos o sea cuando estemos hablando de que si hay que

transferir una transferencia lo que no se puede es empezar a hablar de modelos de modelos no se puede hacer esa es la típica trampa de la izquierda española

izquierda española no tal y como decía evaristo en su

no no es cuestión de eso yo recuerdo una comparecencia del señor

el señor uriarte decía el autogobierno vasco

pero el problema es que lo tenemos aparcado en el garaje y no se hace utilización de ello y luego a continuación decía

únicamente euskal herria bildu cuando ha estado en la diputación de gipuzkoa

pero para responderle al señor bollain es que claro o sea

cada uno decidirá si lo utiliza o no lo utiliza si no hay ferrari en el garaje aunque lo quieres utilizar de un modo u otro no lo podrás utilizar así que las trampas las justas porque yo puedo coincidir en el modelo que vosotros planteáis y en el modelo

pero la cuestión es que independientemente de modelos nosotros no tenemos ferrari

no tenemos nada en el garaje esa es la cuestión eta hori da eztabaida honen arazoa estructural cuando digo estructural yo me refiero a eso señor pastor o sea no tampoco pretendo digo estamos en plena involución estamos en plena involución con un tablero político

la derecha en españa os tiende una trampa

que no podéis salir hay una recentralización absoluta

de duros recortes sociales a la población pero la derecha le da cobertura ideológica en base a valores constitucionales cuasiuniversales

y ahí es la trampa de la que el psoe no puede salir ese es el problema entonces por eso digo no hay tercera vía

entonces estamos en plena involución estamos en una fase en la que no va a venir nada más del estado español y entonces en consecuencia

tendremos que pensarnos algo eta egibar jaunari bizpahiru gauza claro

si estamos valorando que después de siete años de bloqueo hayan venido si les estamos aplaudiendo a eso

estatu espainolak puede decir bueno esperamos otros siete años porque luego ya cuando vayamos

nos van a aplaudir podemos esperar siete o diecisiete años porque luego nos aplauden

denuncia que hayan tenido que pasar siete años para que nos den una cosa orduan

por la ciudadanía vasca lo decidido hay que

eusko jaurlaritzak eta bai espainiako gobernuak al mismo tiempo también decir que no hay que engañar a la gente se trata del derecho a tener la competencia sobre la parte que afecta a euskadi la parte que afecta a vascos y vascas y a un sistema de protección público compartido ahí

recoge nuestro estatuto decía el señor damborenea que no conoce a nadie que esté en contra del sistema público de pensiones o del régimen de la seguridad social yo sí conozco a gente pero si tú

la cuestión ahora mismo es que existen dos modelos que están en pugna

un debate ideológico entre dos tipos de modelo un modelo basado en sistemas públicos de reparto como el que tenemos actualmente mejorable pero como el que tenemos actualmente y frente a otro modelo complemente en frente basado en un sistema mixto

que mantiene las pensiones y otras coberturas públicas en niveles insuficientes para que tengan que ser completadas con planes privados para poder tener una cobertura digna

público es un sistema insolidario es un sistema injusto y sobre todo es un sistema que deja fuera de la protección a las personas que menos dinero tienen que menos recursos tienen

que no se puede hablar de modelo cuando estamos hablando de transferencias

porque lo diga usted literalmente lo ha dicho pero precisamente nosotros décimos lo contrario nosotros décimos que no se puede discutir de la transferencia

luego pasa si no como pasó con lanbide se transfiere sin hablar de modelo y al poco rato tenemos a todos los sindicatos denunciando

de modelo porque a lo mejor

ferraris podríamos hablar de bicicletas

ofensivo señor urruzuno claro que hay un problema de modelos claro que lo hay

los conflictos en clave territorial nacional nacionalista como se lo quiera llamar pero hay un problema de modelos es decir por qué este país vasco fuera independiente no quiere decir que fuera a ser más justo ni más progresista

es que por mucho que exista una pulsión no en españa

por desgracia de movimientos reaccionarios cada vez más existen modelos claro que existen modelos de izquierdas y de derechas

ustedes que han pasado de ser unos iluminatis con perdón de la palabra a unos judíos conversos al estatutismo cosa que me extraña pero que agradezco

porque yo le puedo comprar esa parte de que tenemos un ferrari con el autogobierno claro que tenemos un ferrari con el autogobierno es que ustedes decían que no había ni garaje ni coche

ahora están en otra tesis yo me alegro muchísimo de que estén ustedes en otra tesis pero como estamos en la que estamos y creo que es un buen instrumento vamos a sacarle el máximo provecho posible eso es lo que nosotros hemos querido recoger en la enmienda y mí no me duelen prendas el señor egibar hace una interpretación que dice el estatuto

que aparecen recogidas en el mismo informe y todo juega

todo juega pero me parece importante y por eso lo hemos firmado que aquí

de representantes políticos que avalen la importancia que para este parlamento y para el país vasco tiene que esa transferencia llegue

a este país no le voy a contestar al señor damborenea porque creo que no vale la pena porque

a la legalidad y a la constitución aunque a veces oyendo a algún representante del pp parece que sí las tienen pero en fin

un poco más serios que ustedes y desde luego más inteligentes a la hora de plantearlo eskerrik asko pastor jauna

ezkerrak hemen sistema bat daukagun una pregunta quién es el responsable el responsable político único eso sí que es único además de la caja que no aparece en ninguna previsión constitucional ni estatutaria tal denominación quién es el responsable único de la gestión del régimen económico de la seguridad social porque parece que de su ruina

se habla aquí especulando sobre como si tuviéramos un sistema propio e independiente

son cortinas de humo para evitar abordar la transferencia de la competencia después de treinta y nueve años largos

unitario del sistema que aparece también en las fichas y también el principio de solidaridad

es que nosotros entendemos que se tiene que transferir un sistema no enfermo no un sistema inviable que el responsable de la situación actual

podemos aducir razones de crecimiento de la esperanza de vida

contingencias que evidentemente hay que abordar pero el responsable no es el gobierno vasco no son las instituciones vascas sin embargo el artículo dieciocho punto dos y la transitoria quinta dan para establecer

en los que evidentemente en euskadi en el régimen económico de la seguridad social el gobierno vasco tendría una capacidad ejecutiva ejecutiva para qué

pues desde el reconocimiento y la capacidad para recaudar cuotas y pagar las prestaciones para

que eso es lo que está previsto capacidad de vigilancia y supervisión y evidentemente

y ya sabemos que hay factores que están incidiendo en la viabilidad del sistema pero también es verdad que los vascos y vascas

y durante mucho tiempo al sistema y esos vascos que han cotizado no son responsables de la gestión fallida de los distintos gobiernos

el ratio de desempleo que tenemos en este país el alto porcentaje actual de cotización con bases máximas

el tejido empresarial que tenemos una estructura también económica diferenciada nos hace pensar

con las decisiones que haya que implementar evidentemente podemos tener o permitir la articulación de un sistema que sea financieramente sostenible

incluidas las sentencias son convenios después de treinta y nueve años quién es el responsable de que no se haya materializado

las transferencias de esas competencias y ya he citado todas las que son

todas ellas complementarias que por supuesto a una arquitectura de cobertura social e institucional en este país le otorgaría un cuerpo completo

pero se niega la posibilidad y después de treinta y nueve años

la discusión y el posible acuerdo sobre la transferencia del régimen económico de la seguridad social o todas las competencias atinentes a la seguridad social hori da daukagun debatea

el que los distintos grupos con los matices respetables todos ellos firmemos y aprobemos y validemos hoy una posición muy mayoritaria y les invito a ustedes a sumarse a lo que es esa mayoría para que la decisión sea de setenta y cinco parlamentarios y no de sesenta y seis que estamos exigiendo al gobierno vasco

de todas las competencias que afectan a la seguridad social eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta señor urruzuno estamos en plena involución nos dice no sé acaban ustedes de poner un gobierno socialista en madrid

si es un gobierno muy involucionista o no

hágales caso señor pastor no sé si son ustedes más inteligentes nosotros somos más claros décimos las cosas más claras y creo que se nos entiende bien

el problema del ferrari es que no sirve para ir al monte va por carreteras autopistas pero para subir a los montes no sirven los ferrari y señor egibar me alegra que me haya hecho esa pregunta quién es responsable

en su conjunto el partido nacionalista vasco gobernando desde hace cuarenta años en esta comunidad autónoma sí sí

cuarenta años más viejos eso sí también y eso es lo que lo hace deficitaria por supuesto que los vascos hemos cotizado más que otros y por eso tenemos las pensiones más altas

es justo porque para eso han cotizado para cobrar cotizas más cobras más

que sí pero para los cotizantes no para todos los ciudadanos porque si no el sistema es insostenible eh señor egibar cuarenta años más viejo y quién es el otro

por amenazas por eso tenemos la población que tenemos

los vascos fuéramos deficitarios en los temas de pensiones

y yo no le digo que no lo incluya en el calendario negociador pero si nosotros hemos planteado aquí que el gobierno vasco y el señor urkullu vaya a negociar a madrid la transferencia de la seguridad social les hemos dicho con lealtad

y el estatuto y cumpliendo las leyes y las normas y las sentencias del tribunal constitucional o es que usted tiene bula para incumplir las sentencias del tribunal constitucional por qué por qué es nacionalista vasco pues en un régimen democrático se supone que todos tenemos que cumplirlas

esa excepcionalidad eh habrá que pensar que no son muy democráticos

va a durar más que el gobierno de madrid va a serlo porque se van a encargar ustedes de que dure más si se lo he dicho antes si ha sido el partido nacionalista vasco el que durante muchos años se ha negado a recibir las competencias

las políticas activas de empleo porque hubo que cambiar de gobierno y cuando

en madrid con el señor zapatero se metieron ustedes por medio desde el congreso de los diputados si esto lo hemos recordado ya muchas veces señor egibar y que se metieron a entorpecer

a ver los cincuenta millónes de años todos los años

yo que quiere que le diga por qué somos la única comunidad que no ha crecido en población con lo bien que se vive ahora

por qué tenemos menos población ocupada que hace diez años claro menos ocupados menos cotizantes cada vez más pensionistas y encima además ahora tienen la mala virtud de vivir muchos más años

porque osakidetza funciona bastante bien

en otras no señor darpón y lo que son los médicos sí pero el otro no claro

que es obvia pero si este debate lo tuvimos el primer día de esta legislatura

si también lo tuvimos ayer en los presupuestos todo eso es lo que no es prioritario para este gobierno eskerrik asko damborenea jauna

hoy traemos a debate la moción consecuencia de la interpelación al lehendakari del pasado veintitrés de noviembre

en diferentes nombramientos llevadas a cabo desde el servicio vasco

osakidetza es mucho más que una oferta pública de empleo mucho más decía el lehendakari el pasado pleno de control y menos mal me siento en duda con una osakidetza que merece nuestro conocimiento como institución pública y profesional por encima de una oferta de empleo mejorando cada día sin duda pero también reconociendo el servicio público de calidad que ofrece y transfiriendo confianza continuaba y sin embargo la apuesta del señor darpón como máximo responsable del departamento de salud ha sido clara apuesta por privatizaciones

que tras declarar el tribunal superior de justicia del país vasco nula la privatización de los servicios de cocina lavandería y limpieza

pero no solo eso el departamento de salud mantiene la privatización de las ambulancias que prestan su servicio a niveles alarmantes todas las ambulancias de emergencias son gestionadas por empresas

también sin embargo no sé si le preocupa las condiciones en las que se desarrollan los servicios ni la precariedad en la que estos trabajadores están sometidos más

la osi de tolosaldea cuenta con un hospital privado la asunción como centro de referencia

los servicios informáticos son gestionados en un noventa y cinco por ciento por empresas privadas en relación a las políticas de recursos humanos se apuesta claramente por contrataciones temporales para cubrir puestos que son estructurales nombramientos de jefes de servicio manipulados para favorecer intereses particulares como el denunciado a fiscalía por parte del anterior jefe del servicio de

por tratarse de una candidata con label o la no cobertura de las it del personal

un aumento innecesario de las cargas de trabajo en su apuesta por el desarrollo profesional no solo paralizó de manera arbitraria su propia convocatoria del dos mil once si no que se niega a cumplir la sentencia que le obliga a pagarla anunciando su recurso

de dinero público además la paralización de sucesivas convocatorias desde el dos mil once ha generado

dependiendo del nivel alcanzado hasta dos mil once también ha sido últimamente muy debatido la gestión de las emergencias planes de unión en un solo centro coordinador que provoca la dimisión de sus gestores nula negociación con la junta de persona lleva un año reclamando la equiparación en muchos aspectos con el personal de osakidetza en relación a la atención primaria de lo que debe ser la sanidad pública está abocada a la práctica desaparición por la creación de las osi

cuando la media europea es del veinticinco por ciento hay que añadir la nula planificación de sus recursos humanos generándose una insuficiente cobertura entre el personal médico y de enfermería

de generar planes de salud que tengan en cuenta las condiciones sociales nos encontramos con consultas saturadas estos son algunos de los problemas domésticos que tiene el señor darpón en relación a lo que debe de ser una apuesta clara por la sanidad pública

ha dejado además al descubierto la dedocracia y el clientelismo

el señor darpón nunca ha querido investigar nada ya lo hemos dicho en la anterior en el punto dos

porque ya conoce de sobra el modelo igual lo responsable hubiera sido haber aceptado que de siempre ha sido así y que era el momento

sin embargo optó por la estrategia de la mejor defensa es un buen ataque hacia los que denunciábamos el fraude de sus ope y a negar que esto ocurriera en el segundo punto el orden del día de hoy como decía de este pleno ya hemos mencionado y detallado cual ha sido la actuación tan

actitud deplorable e irresponsable en tiempo y forma investigaciones arbitrarias de unas categorías sí y otras no en base a criterios subjetivos hubiera abierto algún tipo de expediente informativo si las ope dopadas no saltan a los medios de comunicación

repetimos repetimos los exámenes en tres categorías por problemas de modelo de corrección utilización de mayúsculas y justificaciones a derecha alguien se ha creído esto

y se chocó con todos los recursos interpuestos así que lo siguientes expedientes abiertos se resolvieron sin problemas proponer un nuevo modelo de ope que le permitiese cerrar en falso sin haber investigado hasta el final

sin depurar ningún tipo de responsabilidad y sobre todo sin ningún diagnóstico que de pista de qué es lo que hay que cambiar es decir un nuevo intento

siempre ha habido filtraciones en las pruebas de especialidad porque lo que sí ha demostrado el consejero es que es la publicity

lo que quiere tener controlado y para ello no ha reparado en gastar dinero público para distraer a la opinión pública un dinero público

pediátricos y que supondrá una inversión muy inferior a los doscientos siete mil euros gastados en la celebración del aniversario tan redondo como el treinta y cinco una inversión de treinta mil euros es lo que vale un respirador infantil

a manifestar su indignación por la ineficiencia y mala gestión del consejero en su departamento y del mismo modo instábamos al parlamento a que se le reprobase

dopadas pese a quien pese a elkarrekin podemos

mantenga este prestigio que tantos profesionales han ayudado a alcanzar

basado en el buen trabajo y la buena gestión y no solo en campañas publicitarias por cierto en ese empeño que hacen últimamente

he de agradecerles que nuestra iniciativa de poner en marcha un proyecto de fisioterapia en la atención primaria haya tenido tan buena acogida
y como todo lo demás está dicho en el punto segundo y es hora de comer no me entretengo más mila esker eskerrik asko macazaga

la señora macazaga en su intervención que yo la verdad la esperaba

cuestión a primera hora muchos de los argumentos entiendo que la proponente

pero sí que es cierto que los últimos minutos se han ceñido más bien a hablar de las irregularidades de la ope que la primera parte de su intervención

cuestiones que algunas podemos compartir y otras no de la gestión del departamento y en este caso del consejero de salud como su máximo responsable decía al final de su primera intervención señora macazaga y me van a perdonar la voz que igual tienen que recaer

de la petición del partido popular de asumir responsabilidades concretas en la persona que ostentaba la máxima responsabilidad de la dirección de osakidetza es decir la directora general de osakidetza yo le quiero decir ahora

antes que ya veremos igual sí igual no veremos obviamente cómo se desarrollan los acontecimientos y que este grupo como creo que ha quedado meridianamente claro en nuestra primera intervención

usted en su iniciativa plantea en dos párrafos por una parte la depuración de responsabilidades pero tengo que decirle que sí se han depurado responsabilidades no sabemos si las suficientes o no eso el tiempo lo dirá y desde luego este grupo no está cerrado

cómo se desarrollen los acontecimientos fruto de si este gobierno aprovecha la oportunidad que en este momento tiene la oportunidad de hacer un cambio radical

así como anunciar un cambio también de restructuración de la dirección de recursos humanos

decisiones o presentaremos más iniciativas al respecto por lo tanto señora macazaga hasta la fecha sí se ha asumido una responsabilidad cuando este gobierno el consejero

estaban dispuestos hasta ese momento aunque el partido popular puso encima de la mesa a través de una iniciativa la necesidad de asumir responsabilidades que se concretaban en la persona que ostenta la máxima responsabilidad de la dirección general de osakidetza

del partido popular porque hasta ese momento ningún otro grupo con representación en esta cámara especialmente me dirijo a ustedes los grupos que están haciendo oposición en este tema habían planteado una iniciativa concreta para que el gobierno asumiera responsabilidades fue el partido popular el que en un texto concreto

responsabilidades concretas en la persona que acabo de señalar usted nos habla en segundo párrafo de reprobación pero también

lo hilo con lo que le acabo de decir nosotros ya registramos una petición

de octubre estaba cesada ya la directora general de osakidetza estaba cesada porque obviamente este gobierno entendió

que tenía un grave problema y que se tenían que asumir las responsabilidades correspondientes

y creo que tenía que ser así yo lo he dicho en mi primera intervención esta parlamentaria ha preguntado en reiteradas ocasiones y a la propia directora general de osakidetza y lo vuelvo a repetir quién de la dirección de osakidetza proporciono la lista de las personas que elaboraron los exámenes al ivap

no contesto a esta pregunta por lo tanto señora macazaga a día de hoy nos satisfaga más o menos y en virtud de todos los hechos que hemos conocido de las investigaciones realizadas y de las conclusiones también que hemos tenido ocasión de analizar y de forma exhaustiva

el gobierno ha actuado tarde mal ha impulso de la oposición y específicamente del partido popular que fue quien puso encima de la mesa la concreta el concreto cese de la directora

tengo que recordar como lo he hecho en mi primera intervención nosotros hemos sido muy críticos con la actuación de los responsables de la sanidad vasca tanto con el consejero como la directora creo que en un primer momento se trataron de ocultar la gravedad de estos hechos de minimizarlos

también otros estudios que han resultado ser ilustrativos pero obviamente el gobierno

dirección de osakidetza tenía que realizar otras actuaciones que nosotros también exigimos

efectivamente se ha actuado tarde pero se ha actuado y se ha actuado también hay que decirlo a rebufo de los acontecimientos y es cierto que este departamento y este gobierno pues ha sido superado por los propios sucesos y por propio desarrollo

conociendo efectivamente la actuación y lo he dicho en mi primera intervención de los responsables del departamento y de la

en relación con las irregularidades y las evidencias de filtraciones en relación a esta ope ha sido muy deficiente y al final

las comparecencias y las manifestaciones concretas cuando este grupo hablaba del esclarecimiento total de los hechos y en su caso de la depuración de las responsabilidades que correspondieran cuáles eran las manifestaciones tanto del señor consejero como de la directora general de osakidetza y vuelvo a repetir aquí y

ni se dignó a contestar a preguntas que efectivamente creemos que ella tenía una respuesta como máxima directora de

este gobierno y el propio lehendakari porque el propio lehendakari y el propio consejero toman la decisión de cesar

de la mesa la asunción ya de una vez por todas de responsabilidades concretas y se vio compelido por lo tanto a asumir esa responsabilidad

esta petición de asunción de responsabilidades y nosotros como he dicho en mi primera intervención creemos que el gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad esta no es una oportunidad cualquiera en este momento hemos conocido

está pendiente de conocer los nombramientos en la dirección de recursos humanos

qué decisiones toma vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones que se están cursando en el entorno de la fiscalía y en el entorno del ararteko y sin perjuicio obviamente de que

haya que tomar más decisiones este grupo no se cierra a tomar más decisiones pero creo que es en este momento oportuno y en un ejercicio también de seriedad

una vez que se ha asumido una responsabilidad política no en cualquier persona porque podía haberse cesado al director de recursos humanos

se cesó a la responsable de osakidetza a la directora

múgica por lo tanto esta es la oportunidad que tiene el gobierno

esperemos que la aprovechen no pierdan el tiempo y tomen las decisiones que tengan que tomar desde luego para que la sombra de duda que haya podido

muy prestigiado por los ciudadanos vascos gracias a la labor

público de salud desde luego no quede la menor sombra de duda sobre el sistema por eso nosotros tengo que decir que

reprobar al señor consejero en su iniciativa original pero luego en la transacción

con podemos sí hablan claramente de reprobación pero nosotros hemos planteado nuestro propio texto que dice lo siguiente instamos a dar cumplimiento al acuerdo del veintiuno de junio en el que el gobierno empezó a reconocer los hechos y que había irregularidades instamos al gobierno

se realice un cambio radical en la gestión de este ente y especialmente en la política de recursos humanos señor consejero que le digo que estaremos muy atentos a las decisiones que se tienen que

de forma inminente en relación a la dirección de recursos humanos porque hasta la fecha no hemos conocido cambios esperemos que se vayan conociendo los cambios en la línea que se comprometió este gobierno en la dirección de recursos humanos y también instamos al gobierno a colaborar con las investigaciones de las irregularidades de esta ope a adoptar todas las medidas que sean necesarias para esclarecimiento de los indicios

porque hay indicios evidentes de filtraciones aquí los aprobados están agrupados

en torno o en el entorno de ciertas personas que han hecho los exámenes que además casualmente algunas de ellas han sido miembros de tribunales señor darpón señor darpón y

de tribunales y obviamente como he dicho antes

de en su caso las nuevas responsabilidades que se tengan que depurar besterik gabe eskerrik asko anuncio que en la transacción

y por insuficiente y porque creemos obviamente que no hay nada de exigencia
en el texto planteado por el pnv y partido socialista pues votaremos en contra eskerrik asko garrido andrea

gracias presidenta y buenas tardes a todos esta moción responde a una serie de iniciativas por parte del grupo elkarrekin podemos en la que lo que

de una forma más clara y otras se dejaba entrever desde que surgió este asunto elkarrekin podemos ha presentado dos interpelaciones una pregunta oral cuatro preguntas

y dos mociones cada una de las iniciativas han sido trastadas en la forma que requerían pero es cierto que todas ellas tenían un mínimo común daba igual lo que se acordará lo que se contará lo que se debatiera lo que se propusiera

antes si quiera de que se suscitaran los debates por tanto empezaré por plantear aquellos puntos en los que estamos de acuerdo que creo que son algunos no puede volver a suceder lo que ha ocurrido en torno a esta ope segundo hay que ser capaces de garantizar igualdad de oportunidades para quienes se presenten a un examen lejos de sospechas y con unas clasificaciones que respondan al esfuerzo de quienes acuden a una oposición tercero debemos trabajar por mejorar el sistema

y ahora tenemos la oportunidad de trabajar para mejorar esto hay un documento sobre nuestras mesas sobre el que aportar y trabajar y cuarto los diferentes grupos políticos hablamos de la necesidad de asumir responsabilidades y consideramos que se han asumido

pero para lograr los objetivos entendemos el grupo socialista que no todo vale no vale hacer afirmaciones genéricas que se sustentan en interpretaciones

en algunos casos y que no se pueden dar como casos puntuales no se puede trabajar en política en torno al cuanto peor mejor y no debiéramos de utilizar intereses partidistas dando igual lo que queda en el camino y qué queda en el camino en este caso opositores profesionales de osakidetza como telón de fondo

podríamos volver a repetir lo que ya hemos dicho en innumerables ocasiones incluso que hemos repetido en el primer punto de este pleno

así que tomaré la iniciativa presentada y me centraré en ella en la justificación usted señora macazaga dice textualmente que desde el departamento no se ha actuado

así tal cual creo que de verdad no puede creer esto que escribió en la justificación

o que lo considere insuficiente o que lo entienda equivocado pero creo que hay cosas innegables el gobierno ha comparecido a petición de los grupos de la oposición a petición de los grupos que apoyamos al gobierno incluso a petición propia se ha reunido con cada uno de los grupos parlamentarios a puerta cerrada para tratar

de forma rápida y con información lejos de la opacidad al que se le acusa ha actuado de diferentes

al debate y a la negociación trabajando para esclarecer el tema y facilitando como no podía ser de otra manera la documentación que se exigía por parte de los diferentes grupos parlamentarios

se asumió como no podía ser de otra forma la dimisión de la señora múgica y nunca se ha negado la existencia de una situación no deseable que merece una solución

definió que tenía un problema en una de las comparecencias antes del verano entendemos

que ha trabajado en el intento de esclarecer lo que ha sucedido como he dicho a través de iniciativas parlamentarias de comparecencia de trabajo interno de reuniones con todos

para cambiar que parece no ha funcionado se pusieron en marcha tres investigaciones la del ararteko la de la fiscalía y dentro del propio gobierno pero nada sirve parece que nada sirve y la verdad es que para este viaje casi podía haber presentado esta iniciativa allá por el mes de junio pero entendemos que entonces el candelero no hubiera actuado a su servicio el grupo parlamentario socialista tiene mucho respeto a esta cámara

una hoja de ruta que entendemos que elkarrekin podemos también votó y exigimos que se cumpla pero de qué sirve debatir y acordar si luego no respetamos nuestros propios acuerdo

estamos en un momento en el que no sé si nos escuchamos unos a otros para poder llegar a acuerdos no sé si merece mucho la pena seguir discutiendo porque creo que nadie va a cambiar de postura

esperan una respuesta como algunos decían esta mañana que seamos capaces de solventar este enredo que se asuman responsabilidades

con todo lo dicho entenderán que vamos a votar que no a su moción y lo único que espero es que seamos capaces de sentarnos a trabajar para mejorar lo que ha fallado osakidetza es una institución que al menos era la mejora valorada de la ope es un ejemplo en el que otros se miran con carencias también es verdad con necesidades de mejora solo faltaba pero que funciona que crece y que resuelve el señor darpón hoy es el objeto de esta iniciativa en el que se le pide bueno que al final era lo que a ustedes más les preocupaba pero yo creo que el

por poner un socialista es coyuntura bengoa se fue y el señor darpón llegará un momento en el que decidirá

pero el sistema público de salud deberá seguir funcionando y además bien

este debiera ser nuestro objetivo lejos de pretensiones partidistas nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

la transaccional que han acordado me parece un poco temerario y también me parece un poco peligroso estar continuamente

el sistema que tenemos de acceso de los profesionales de los médicos de los especialistas en osakidetza porque parece que están continuamente extendiendo la sospecha convirtiendo sospechas en pruebas y basando toda esta especie

en que no ha sido posible demostrar que no ha habido filtraciones me parece un poco temerario un poco peligroso porque desvirtúa exactamente

que ha habido filtraciones pero al igual que no ha sido posible probar que no las ha habido entonces por eso

a que de una vez por todas a que viniera a esta tribuna y de una vez por todas

tiene ese conocimiento datos personas concretas para poder avanzar en esas investigaciones que según ustedes no son suficientes a día de hoy

luego sería capaz de dar la cara frente a todas esas personas sería muy interesante favorecería mucho

demandan en cualquier caso y en relación también con la iniciativa anterior lo que no puede ser es ser a la vez acusación y juzgador

antes hablábamos de crear una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades y aquí estamos ya diciendo que hay

porque no ha sido capaz el consejero de demostrar que ha habido filtraciones o aclarar

por lo tanto nosotros no compartimos cuando se dice que la gestión ha sido ineficiente

no vamos a votar a favor de esta transaccional entendemos

parece que no es suficiente porque algunos saben que han existido filtraciones

con informes con informes objetivos de catedráticos de otras universidades de otros sitios

en todo caso este tema les ha servido como excusa perfecta para arremeter tanto contra el gobierno vasco y de paso contra el partido nacionalista vasco de hecho ha quedado muy patente la pugna que existe entre los diferentes partidos de la oposición

el que más arremete de todas formas nosotros estamos abiertos a la crítica a la crítica

de trazo grueso nosotros tenemos voluntad de mejorar qué no se ha cumplido de esos siete puntos

qué es lo que no se ha cumplido realmente son preguntas

que no tienen respuesta la voluntad de colaborar

es patente en la investigación misma se ha puesto a disposición de todos los grupos de la comisión de seguimiento del ararteko de la fiscalía toda la información disponible toda la información ustedes cuentan con la misma información que puede tener el gobierno o que podemos tener nosotros las medidas de mejora ya tenemos un documento para trabajar si ya hemos tenido una comparecencia

en oposiciones y en función pública y ha hecho su propuesta ya tenemos una base en la que trabajar ganbera honetan esan dira gauzak benetan ikaragarriak si el rigor de los argumentos de algunas cosas que se han dicho en esta cámara es como el de que osatek es una empresa privada

esan da que no son las tres especialidades que son todas y además desde siempre en las que ha habido fraude y filtraciones esan da

enpresa pribatura joan direla que se ha echado

a la empresa privada eso qué quiere decir que los que están no son los mejores especialistas o sea si lo entendemos así es un contrario los que están esos mejores especialistas es lo que está diciendo es lo que está afirmando talde bereko

eta besteak esaten du que al consejero le han metido un gol unos cuantos jefes de servicio nola uztartu daiteke hori

sobreak hoteletako kedadak mehatxuak esa es la realidad un ciudadano normal que acude a osakidetza pues no eso es una deformación de la realidad

todos los días del año y las personas que van porque necesitan un servicio en osakidetza ellos

duela porque es cierto que las investigaciones arrojan indicios y se adoptan medidas

pero no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo otra cosa es la intención de utilizar políticamente

esta situación esta exageración por eso

vamos a apoyar nuestra enmienda en la cual pedíamos como hemos hecho anteriormente que el gobierno vasco y el departamento se reafirmen en su compromiso por aclarar e investigar

en colaboración con la fiscalía por ejemplo con el ararteko por ejemplo que se finalice la ope con todas las medidas con todas las garantías con total transparencia y que además o se trabajen las nuevas medidas para que en el futuro no pueda volver a pasar

yo ya pedí el cese al lehendakari en comisión y no creo que se trate precisamente de hacer una carrera señora garrido pero quiero recordarle que la señora múgica

del país vasco señora rojo dígame qué responsabilidad se ha depurado qué responsabilidad ha depurado el gobierno porque es dimisión múgica o es cese

en su réplica quiero que me explique también porque lo ha vuelto mencionar la investigación del ararteko y quiero saber qué está investigando el ararteko señor

hoy ha dejado claro que se ha revisado todos los libros de sesiones pero le ha faltado escribir el discurso decide

a su consejero y por otro lado que hubo filtraciones no lo digo yo lo pone

en fin lo que elkarrekin podemos cree que desprestigia a una institución

es que las plazas de funcionario se otorguen a dedo y que esto se haga con el beneplácito de un gobierno

es que los profesionales que la forman tengan que estar sometidos a esta prácticas corruptas de selección de personal

no se garantice un derecho básico al acceso en la función pública como es la igualdad de oportunidades osakidetza tiene un prestigio labrado por miles de profesionales salidos

como esta porque no les quedaba otra opción que aceptar el modelo

que hasta la fecha han esperado turno

acceder a la función pública por mérito y capacidad señor orbegozo entretenernos en el tú más y tú menos pero lo que está claro es que hubo filtraciones de la ope lo dicen

y el consejero de salud no ha investigado y no ha investigado

es tapar sus vergüenzas como aquel emperador y eso es lo que por eso

la medalla pero sus palabras y su actuación y sus hechos en el día de hoy

suenan son bastante ridículas y suenan desde luego dejan mucho que desear pero si quiere colgarse la medalla cuélguesela por nosotros y estupendo

de colgarse una medalla y este grupo y esta parlamentaria desde luego no ha pretendido colgarse

créame señora ubera que cuando un grupo y una parlamentaria en concreto pide

mire este grupo no va de la mano de nadie este grupo ha escuchado a muchas personas antes de tomar cualquier decisión en relación a esta cuestión

a raíz de una petición concreta de asunción de responsabilidades que se concretaban en el

luego habrá que ver porqué se corrige el boletín oficial el anuncio primero y se pone cese a petición propia pero seguramente habrá tenido

boletín fue un cese en toda regla y al final el cese de la directora general de osakidetza no sé si alguno les parece suficiente o no

de momento nos parece que es la asunción de una responsabilidad suficiente por el momento eso no quita para que en un futuro y ahora que está el lehendakari se lo puedo decir en persona y ante esta nueva oportunidad este gobierno cambie el rumbo de la gestión de osakidetza y se cambien las cosas en la gestión de osakidetza haya un nuevo director que además es de la persona es una persona de confianza del entorno del lehendakari y también

de esa dirección donde no se ha abordado con la suficiente diligencia muchas de las cuestiones y de los problemas que se han suscitado en torno a esta oferta de pública de empleo pero tengo que decir mire señora ubera yo no

es más cuando vinieron los periodistas y nos preguntaron por nuestra iniciativa

exactamente a algunos de ellos a ver qué había dicho usted y cuando me dijeron que había pedido responsabilidades políticas algunos de ellos yo les preguntaba pero qué responsabilidad política ha señalado y me contestaron

y me dice sí nos ha sorprendido porque vosotros en vuestra iniciativa concreta pedís

ocasión de oír su rueda de prensa sí tuve ocasión luego de leer y de forma exhaustiva los teletipos y tengo que decirle que usted no pedía ninguna responsabilidad concreta si a los hechos nos remitimos

de petición de una comisión de investigación en julio a finales de julio y usted la activa en este momento y se activa en este momento cuando podemos introduce en este orden del día la moción que viene en consecuencia de una interpelación y la moción

también viene después de la interpelación del partido popular en donde viendo que la situación estaba siendo insostenible no viniendo de la mano de nadie y escuchando a todo el mundo

lo que nosotros no queremos cuestionar el sistema y tampoco cuestionar a una categoría médica muy concreta que creemos que además

hacen que tengamos uno de los servicios más valorado y creo que algunos de ustedes también ha estado muy centrados en cuestionar a una determinada categoría médica y también tengo que decir aquí con muchas declaraciones suyas en muchas ocasiones muy injustas y que no se ceñían a la verdad también de los hechos

que fue cesada de su cargo hombre estamos hablando de la mayor empresa pública de euskadi estamos hablando de la empresa que tiene el mayor número de trabajadores estamos hablando de treinta mil trabajadores

han tenido ocasión de ver apuntaban directamente a que había

y por eso este grupo solicitó el cese de esta persona ustedes podían haberlo hecho igual que nosotros

que no la ha pedido la ha pedido a raíz de una enmienda de transacción yendo de la mano de bildu usted podía haber activado su comisión de investigación estos cinco meses

hasta que se debate la interpelación de grupo popular hasta que el grupo popular a raíz de su iniciativa

plato de buen gusto para nadie y no para este grupo y menos para esta parlamentaria tampoco

de osakidetza luego viene la interpelación de podemos luego viene la moción de podemos y luego usted activa la comisión pues señora ubera demasiadas casualidad la verdad por los hechos usted misma mire

con dos cuestiones concretas pues bajo a esta tribuna de forma responsable a responderle a usted aunque en fin creo que no soy yo la persona que se tiene que interpelar qué tipo de responsabilidad es hombre señora macazaga

yo entiendo que es la asunción de una responsabilidad que no es la que ustedes querían

que hubiéramos llevado a la gente a la plaza del pueblo porque no les parece suficiente en nada pues me parece pues bueno respetable como todo lo que es respetable que se diga en esta tribuna

presente su dimisión que la señora laura garrido dice que no fue dimisión que fue cese que aparece en el boletín que si no lo único que sabemos es que hoy por hoy

que era la máxima responsable de la institución por lo tanto eso es asumir una responsabilidad

y señora ubera yo tampoco me alegro porque creo que el triunfo de esto hubiera sido que no tendríamos que estar debatiendo de esto y por tanto mi grupo tampoco se alegra ni de que no esté la señora múgica si fuera cese dimisión o como fuera aquello

mire señora macazaga es que creo que usted debiera leerse la hemeroteca porque la primera parlamentaria que habló de la investigación del ararteko fue usted poniéndolo en valor diciendo fíjese el lio que tiene el gobierno

por tanto no me pregunte a mí de qué estoy hablando el ararteko abre

de oficio la primera semana de junio lo publica los periódicos el día siete

para analizar la situación generada por las presuntas irregularidades en las ope de osakidetza habla de posibles filtraciones porque el ararteko quiere tratar el tema de las actuaciones de osakidetza y de las del ivap

pregúntese usted de qué hablaba cuando usted puso en valor la investigación del ararteko

como es el replanteamiento de la reprobación a un consejero y este debate señor darpón ha salido usted el qué mejor

sobre quién presenta la primera quién es más agresivo quien es menos con el gobierno

que en algo que ustedes han tildado del mayor escándalo que ha ocurrido en el gobierno vasco se ha convertido

en la que se ha hablado de todo menos de lo que ustedes habían venido a debatir por lo tanto ha ascensión de responsabilidades de forma directa por quien era la directora de osakidetza

conocía y desde luego que todos los temas deben ser tratados de una forma seria pero cuando alguien lleva seis meses trayendo todas las semanas una iniciativa para el que tema no muera y seguir permaneciendo en el candelero de los medios de comunicación cuando menos

a los grupos de la oposición les ha faltado un poco de seriedad porque han hablado de todo

está claro que no era una competición entre los grupos de la oposición verdad ha quedado muy claro en cualquier caso perdone señora macazaga por prepararme los temas por leerme el diario de sesiones lo que se ha dicho cuántas intervenciones ha habido

perdone pero por lo menos me suele gustar prepararme los temas

muchas gracias presidenta señorías lehendakari consejero bueno les daré una alegría porque hay un acuerdo hay un acuerdo en este punto

en la explicación la verdad que seré breve y precisamente las cinco personas

que vamos a intervenir supongo y que firmamos esta enmienda de transacción pues tuvimos la

asuntos europeos de estar recientemente en bruselas en un viaje parlamentario y estar

con responsables de comunicación y miembros de la eurocámara se constató

importante déficit en lo referente a la información que los medios de comunicación públicos y privados dan sobre la actualidad de la actividad de las diferentes instituciones de la unión europea asimismo y ante unas elecciones trascendentales

y de las nuevas características además de la forma de actuar de la unión han cambiado mucho las cosas desde dos mil catorce a dos mil diecinueve

de los candidatos y de las candidaturas cuestiones que tienen que ver con la aprobación presupuestaria

incrementar la información que fruto de la actividad de las instituciones políticas debe llegar al ciudadano

fundamentales que pudimos comprobar estuvimos con responsables

la política europea además eso tenemos que decirlo lo sabemos todos influye y determina cada vez más el futuro de las actuaciones públicas y de las políticas de los estados miembros

como la nuestra y por ello de los ciudadanos las próximas elecciones europeas del dos mil diecinueve serán importantes pero también el día a día

quiero decir que hemos llegado a un acuerdo en relación con lo que he comentado y hemos hecho una serie de instancias a los medios de comunicación que son

actores institucionales o sociales importante referencia a la hora de transmitir precisamente la importancia de todas esas cuestiones al ciudadano hemos llegado a una

al ente público de radio televisión vasca e i te be y a su consejo de redacción a reforzar la programación informativa

la actualidad de las instituciones de la unión europea incluyendo dentro de los programas informativos y de actualidad de forma habitual las actividades y el trabajo de las distintas instituciones europeas

la programación ante las elecciones europeas de mayo de dos mil diecinueve algo que desde luego es necesario y entendemos que está bien orientado a nuestro medio de comunicación publico

adquiere asimismo el compromiso de explorar o reforzar vías para acercar dichas instituciones

responsables públicos y políticos y en esas claves este parlamento

a la dirección de los servicios informativos de otros medios públicos también de radio televisión española

la información relativa a la actividad de las instituciones de la unión europea con especial protagonismo las europeas de mayo de dos mil diecinueve que vuelvo a decir tienen características diferentes

unas elecciones políticas que no van a tener un componente social además mucho más importante que

decíamos también que el parlamento vasco solicite a la dirección de todos los medios de comunicación privados

a la actividad de las instituciones de la unión europea y especialmente ante las elecciones europeas

hemos entendido eran importantes

ha sido muy fácil agradezco a todos los grupos sus aportaciones en relación con

aprobación esperemos que los medios de comunicación aludidos no solamente sean receptivos

responsabilidad social que tienen de ser correa de transmisión

los ciudadanos y amplíen en su programación y sus horarios la cobertura informativa sobre la unión europea y sus instituciones muchas gracias

ez naiz luzatuko decía que el acuerdo

creo que es importante de cara a las próximas elecciones europeas que la información que los medios públicos vascos en este caso hacíamos especial

comunitarios que tenemos que contar también con ellos que es una realidad comunicativa que existe

de la realidad de la unión europea yo creo que es importante que se informe de la pluralidad de opiniones de la pluralidad de actores que

y ante debates que vamos a tener en los próximos meses en la unión europea y que se haga además con rigor

hay que informar bien sobre las distintas visiones que hay de la unión europea porque muchas veces

las instituciones europeas se pretende o se tiende a confundir a determinados extremistas de derechas nazis fascistas o ultraconservadores con propuestas desde la izquierda que son críticas con el modelo de construcción europea pero que desde un profundo

por la mayor integración de los pueblos de europa para construir una europa social no necesariamente esta unión europea sino una integración europea social a las necesidades de la gente y de los pueblos que la conforman el acuerdo está implícito

trabajando en esa línea y sobre todo seguiremos que es lo importante

hay en la unión europea que somos parte de esa unión europea con la posición en este caso de mi grupo profundamente crítica pero profundamente también propositiva en pos de esa nueva europa

acercar la realidad de la unión europea al conjunto de la ciudadanía una ciudadanía que a veces ve europa como algo cercano como

con una importante expectativa y otras muchas veces la ve como un problema como algo alejado y como un espacio en cierto modo incompetente para resolver algunos de los grandes problemas que tiene europa y el mundo esto

de parlamentarios recientemente en bruselas con las instituciones y con los responsables de la comunicación

europa al ser un espacio compuesto por muchos países

único para el conjunto de ellos muchas veces generaban resultados resultados políticos resultados legislativos que eran muy mal tratados en cada uno de los países en función

considerase que quedaba reflejado en esa negociación obviamente los asuntos que se tratan en el unión europea a veces satisfacen más a unos países que a otros

hay que hacer concesiones por parte del conjunto de los países y esto motiva que muchas veces haya una política de cierto silencio en cada uno de los países

no se quiere reflejar ante la opinión pública algunos de los aspectos más complicados o delicados de esas políticas que se aprueban

en este momento más allá de los problemas que tiene la unión europea y que son muy importantes en materia de seguridad en materia de igualdad en materia de ayuda humanitaria en fin en tantos y tantos aspectos de las políticas sectoriales

los ciudadanos europeos entre un cuarenta y un sesenta por ciento de la forma en cómo vivimos viene regulada desde la unión europea regulación que luego se adapta en los países pero que viene ya determinada por los acuerdos que se adoptan en la unión europea sobre esto hay muchísimo desconocimiento y

de poder potenciar la participación ciudadana en los aspectos que nos son comunes en la unión europea es la de acercar lo que en ella se trata lo que en ella se resuelve y hacer que sea apreciado por el conjunto de los ciudadanos europeos

no solamente hay unas elecciones europeas que en los últimos años han contado o en las últimas convocatorias han contado con una participación bastante limitada

muy trascendentales donde se intuye que puede haber una dificultad para conformar mayorías después de esas elecciones

un crecimiento importante de la extrema derecha y también de los euroescépticos donde además se va en una cierta crisis de la propia unión europea

de reino unido y todo esto yo creo que merece un esfuerzo importante sobre todo de aquellos que nos consideramos europeístas y que creemos que sigue siendo el espacio

y para poder progresar en un mundo globalizado porque necesitamos como mínimo

ese tamaño ese musculo de lo que significa la unión europea para poder competir y para poder seguir abriendo camino a las políticas públicas económicas sociales

necesitamos de una forma importante que todos aquellos que estamos a favor del progreso y estamos a favor de la unión europea podamos animar al conjunto de los ciudadanos a participar en esas elecciones

sobre algo que está ya discutiéndose

que son los próximos presupuestos de la unión europea unos presupuestos que son decisivos para el desarrollo industrial para el desarrollo tecnológico para la investigación

la política agraria en fin para infinidad de políticas y por lo tanto tenemos demasiados retos ante los próximos meses desde luego el más ineludible y el más importante de ellos es el de ganar la batalla

y el de ganar la batalla a los que quieren descomponer la unión europea

unos cuantos países y unos cuantos partidos políticos dentro de esos países por eso la iniciativa que presentó el señor barrio que va encadenada con otra que se celebrará próximamente en este parlamento donde en un acto abierto la comisión junto con el gobierno del parlamento la comisión de exteriores convocará al conjunto de los medios de comunicación para tratar

sea mejor de la que está siendo hasta ahora los responsables de la comunicación en europa nos advertían de que salvo un país en toda europa y salvo algunas excepciones

un mal tratamiento y la mayoría de los medios de comunicación hacen un mal tratamiento a lo que sale de esas instituciones por lo tanto es necesario corregirlo es necesario para eso concienciar a quienes tienen la capacidad de trasladar

se resuelve y por eso esa convocatoria y este llamamiento en la medida de las posibilidades del conjunto de los medios de comunicación públicos del país vasco públicos del conjunto de españa o privados

de esta petición y a partir de ahora podamos contar con una política informativa con una comunicación que acerque más a los ciudadanos a sus instituciones que a sus instituciones las hagan más trasparentes y que fortalezca

de esa unión europea en progreso en la que creemos y defendemos los socialistas muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak

porque el acuerdo que ha firmado el parlamento europeo con la forta donde está

es por una parte reforzar la colaboración entre ambas partes entre

autónomos que están en la forta y el parlamento europeo para reforzar la información

y la divulgación de información europea no únicamente la del parlamento también la de la unión europea en general

la del parlamento y la de las elecciones de mayo del año que viene y es cierto también que por una parte

a emitir publicidad gratuita información

asumirá los gastos de lo que es la producción el doblaje

en catalán en gallego y en castellano beraz

bertatik barrio jauna sí gracias

volver a agradecer a las y los portavoces

futuras protagonismos de este parlamento en relación con la cuestión que tiene que ver con europa y los medios de comunicación esperemos que sea fructífero seguro que sí que participe mucha gente y ya aprovechando el espíritu europeo

en una de nuestras capitales en estrasburgo sede del parlamento europeo donde hubo muchas víctimas muchas gracias